buenos días gracias señora presidenta señor lehendakari consejero desde el grupo parlamentario populares vascos teniendo en cuenta la necesidad
de actualizar la legislación vigente en materia de protección de los animales en el país vasco mesedez

eztabaida hasi da eta y de adaptarla a los nuevos requerimientos y necesidades actuales

que se han aprobado hechos estos que el gobierno también comparte hemos considerado oportuno presentar esta proposición de ley de protección y defensa de los animales

relacionada con el bienestar animal y que también pretende dar respuesta a la necesidad de actualizar una ley de protección de los animales vigente desde el año noventa y tres y que después de veinticinco años de vigencia requiere de la oportuna

es en las últimas décadas y como consecuencia de una concienciación de las sociedades cultural y económicamente más avanzadas donde existe una corriente cada vez más extendida que demanda una regulación de la relación de las personas con los animales y en general con los seres vivos de su entorno basada en el respeto y en la protección de estos desde la declaración universal de los derechos del animal proclamada el quince de octubre

se han sucedido reglamentos y directivas comunitarios en esta materia que han contribuido al desarrollo cultural y ético de la sociedad para que se vayan asentando el respeto la protección y la defensa de los animales

en españa y su regulación en el derecho administrativo como derecho

lo que tenemos es la ratificación del convenio europeo para la protección de los animales de compañía

de mil novecientos ochenta y siete que fue autorizada por el consejo de ministros y es el nueve de octubre de dos mil quince cuando

y concedida la autorización prevista en el artículo noventa y cuatro punto uno de la constitución por las cortes generales y que

el uno de febrero de dos mil dieciocho convenio al que se debe adaptar nuestra normativa y que hemos tenido en cuenta desde el grupo popular

esta proposición de ley en el ámbito de la legislación estatal y como reflejo o trasposición de directivas y reglamentos europeos en el ordenamiento jurídico interno del estado cabe citar

animal y la ley treinta y dos barra dos mil siete de siete de noviembre para el cuidado de los animales en su explotación en el transporte

en las que expresamente se excluye a los animales de compañía y domésticos sin perjuicio de otras normas de carácter sectorial u otras de carácter específico como la ley cincuenta barra mil novecientos noventa y nueve de veintitrés de diciembre

jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos pero como les decía no existe una ley estatal que contenga una regulación específica sobre animales de compañía

los legisladores autonómicos quienes están abordando la labor reguladora haciendo propia la preocupación de la sociedad por defender los derechos de estos animales de compañía y domésticos

en el país vasco tampoco hemos sido ajenos a estos movimientos de sensibilización de la sociedad en favor del respeto y protección de los animales y además de la ley vigente de mil novecientos noventa y tres de protección de los animales

se han venido dictando sucesivas normas el decreto ciento uno barra dos mil cuatro de uno de junio sobre tenencia de animales de la especie canina de la comunidad autónoma del país vasco o el decreto ochenta y uno barra dos mil seis

sobre perros de asistencia para la atención de personas con discapacidad dado el tiempo transcurrido veinticinco años

el incremento de actividades económicas y comerciales relacionadas con estos animales el aumento en la tenencia domestica de especies distintas a las tradicionalmente consideradas de compañía y dado el rechazo social al sacrificio de estos animales que la ley vigente lo autoriza

y diecisiete de la ley de protección de animales de mil novecientos noventa y tres por todo esto consideramos necesario dotarnos

actualizado eficaz y garantista en la defensa y protección de los animales de compañía cuya finalidad es profundizar en las medidas educativas y de concienciación social endureciendo el régimen sancionador ante conductas incívicas y crueles para lograr la erradicación de comportamientos de maltrato y de abandono animal por desgracia todavía demasiado frecuentes desde el grupo popular en el texto que proponemos hemos querido ir más allá de modificaciones puntuales a la ley vigente a la ley seis barra mil novecientos noventa y tres de protección de animales

legal actualizado que aborde con carácter integral la regulación de aquellos aspectos relacionados específicamente con los animales de compañía procurando

a la vez que se pretende clarificar y facilitar a los ciudadanos el conocimiento de las obligaciones que deben de asumir y que las ampliamos sustancialmente es compromiso del grupo popular prohibir expresamente el sacrificio de animales en los casos de abandono esté o no identificados y sea cual sea el plazo que transcurra sin que su dueño lo reclame

y a esto el criterio del gobierno ni una sola referencia ni la más mínima referencia esto es parece ser a lo que el gobierno llama integral pregunto el contenido de esta proposición de ley se estructura en cuarenta y seis artículos

cuatro disposiciones transitorias tres disposiciones finales y un anexo que recoge una relación de los animales cuya tenencia está prohibida fuera de los recintos expresamente autorizados en el capítulo

al contenido objeto y finalidad esencial de la ley a su ámbito de aplicación y a las obligaciones y prohibiciones genéricas que afectan a los propietarios y poseedores de animales de compañía se conceptúa a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica

atendiendo básicamente a sus necesidades etológicas procure su bienestar hay que decir que nosotros en el artículo dos

definimos a los efectos de esta ley como animales de compañía a los animales domésticos que las personas mantienen generalmente en el hogar con fines fundamentales de compañía ocio educativos o sociales por ser pertenecientes a especies que cría y posee tradicionalmente y habitualmente el hombre con el fin de vivir en domesticidad en el hogar

que hace la ley vigente que entiende por animales domésticos a efectos de esta ley aquellos que dependen de la mano del hombre para su existencia

dependen están en compañía del hombre dependiendo definitivamente de este para su subsistencia y que son animales salvajes en cautividad aquellos que habiendo nacido silvestres son sometido a condiciones de cautiverio pero no de aprendizaje para su domesticación

domésticos como animales de compañía de compañía del hombre nosotros además décimos que en todo caso tendrá dicha consideración los siguiente los mamíferos perros gatos hurones roedores

y équidos utilizados con fines deportivos o de ocio invertebrados

animales acuáticos ornamentales los anfibios los reptiles las aves

se determine reglamentariamente no obstante lo dispuesto en el apartado anterior

los animales de aquellas especies que se encuentren incluidos en los distintos listados o catálogos estatales o autonómicos de especies con régimen de protección especial amenazadas o de especies exóticas invasoras y cuya tenencia no esté legalmente permitida ni tampoco los que se encuentren asilvestrados en el medio natural

la normativa sobre la fauna silvestre sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal en cuanto a las obligaciones de los poseedores y de los propietarios ampliamos las obligaciones proponemos identificar al animal según la normativa aplicable e inscribirlo en los registros que corresponda podemos entre otras obligaciones contratar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil y muy importante consideramos el apartado de obligaciones

sacrificio cero que la ley vigente lo permite

la ley actual lo permite y dice que las diputaciones forales podrán autorizar a las sociedades de tiro a celebrar competiciones de tiro pichón creemos necesario prohibirlo

un sacrificio no justificado y nosotros apostamos por el sacrificio cero

esto no está prohibido y esto se hace en ocasiones y nosotros creemos que esto es un maltrato de libro prohibimos la venta donación o cesión a animales a menores de dieciséis años sin autorización de quien tenga

esto es una de las premisas que el convenio europeo lo marca y nosotros lo fijamos también en esta proposición de ley en el capítulo segundo se regula fundamentalmente las condiciones de tenencia y transporte

así como las relaciones de estos animales con en el entorno para evitar daños y perjuicios a otros animales o a las personas

se recogen los principios y preceptos básicos sobre el control sanitario la identificación

de animales en los supuestos de abandono o cuando la enfermedad o lesión que pudieran padecer a juicio del profesional veterinario sea compatible con una vida digna

cuarto regulamos los centros establecimientos para el fomento y cuidado de los animales de compañía

de abandonados incluyendo previsiones de su recogida establecimientos para su alojamiento así como las competencias que los ayuntamientos ostentan en esta materia el capítulo sexto hace referencia al papel de las entidades que se dedican a la defensa y protección de estos animales el capítulo séptimo hace referencia a la importancia que tiene dar a conocer

de ley si se aprueba a los ciudadanos a las administraciones con el objetivo de promover una concienciación social en el cuidado y tenencia de animales

entre las diferentes administraciones públicas que ostentan las diferentes competencias en esta materia

de modo genérico la actuación inspectora el régimen sancionador su adaptación a euros infracciones leves graves y muy graves

y acciones reprobables que afectan a los animales de compañía cuatro disposiciones transitorias y tres disposiciones finales además del anexo

o recintos expresamente autorizados en definitiva señorías un texto que pretende el marco integrador de los principios y derechos que deben ser garantizados a los animales más próximos en compañía del hombre y que conviven

cuyo objetivo es fomentar la sensibilización de todos los ciudadanos hacia actitudes responsables y de respeto a los animales y que

reprobables puedan ser sancionadas me voy a referir al criterio del gobierno que

en materia de protección de los animales adaptándola a los requerimientos y necesidades del momento actual

marca el criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley y que viene

cuyo orden lo voy a alterar porque considero que la importancia es distinta a la que propone el propio texto

primero dice la proposición de ley registrada en el parlamento comporta algunos cambios en la regulación actual que suponen un paso atrás desde el punto de vista de la regulación de la materia cabe destacar a ese respecto el hecho de que se refiera solo

y primero decir la palabra integral no aparece en todo el texto de la ley vigente no aparece han tenido que inventar un término para comparar con el proyecto de la proposición de ley que se plantea desde el grupo popular

o derivadas de una concepción errónea tanto de la ley vigente como de la norma propuesta la proposición de ley

según se mire como la ley noventa y tres del veintinueve de octubre actualmente vigente cualquiera que lea como les he leído yo antes con algo de atención los artículos dos punto uno dos punto dos doshirugarrena

y los compare con los artículos uno dos y tres de la ley vigente

que el ámbito de aplicación objeto de ambas normas es exactamente el mismo con independencia de su denominación y además consideramos

se ha aprobado les he hecho referencia a la ley dos mil siete de defensa de los animales

por un lado la ley vigente solo se refiere a los animales domésticos o los domesticados que la ley vigente define precisamente como los acostumbrados a la vista y compañía del hombre y a los salvajes cautivos para que o con el fin de su domesticación o sea para convertirlos en domésticos en cuanto que dependen de la mano del hombre para su subsistencia en la proposición de ley todos ellos se conceptúan como animales

según la definición legal que de los mismos se hace es decir tanto los animales domésticos como aquellos otros que son domesticados o aquellos que el hombre críe o posea con el fin de vivir en domesticidad en el hogar cómo se expresa textualmente en la proposición de ley son y se conceptúan legalmente como animales

europeo de animales de compañía además y para que no quede duda a qué se refiere la proposición cuando señala que se entiende por animales de compañía el artículo dosbigarrena hace una lista y mención exclusiva que yo les he leído aquí

excluyente del ámbito de aplicación pero es que además la propia ley vigente no tiene ningún problema en referirse a todos los animales a los que resulta de aplicación domésticos domesticados y salvajes en cautividad

y así si vamos a la disposición transitoria única de la ley vigente al tratar el plazo de

a la ley dice textualmente los establecimientos dedicados a la cría o venta de animales de compañía

los centros de recogida de animales abandonados y demás instalaciones cuyo objeto sea mantener temporalmente animales de compañía que a la fecha de publicación de esta ley

se establecen dispondrán del plazo de un año para cumplirlos por otra parte como es lógico

proclamar el gobierno es obvio que la ley vigente no es integral en este sentido ambas regulaciones con bastante mayor precisión terminológica la proposición

en su medio natural a una serie de animales que se rigen por su normativa específica o propia

de la proposición y el tres de la ley actual vigente que son las reses de lidia los animales de experimentación las especies acuáticas pesqueras

especies cinegéticas etcétera en definitiva la proposición de ley contrariamente a lo que manifiesta

en la regulación de la materia muy al contrario resultan una normativa más avanzada exigente y moderna que la vigente

es seguro que supone un paso atrás en la regulación de la materia es dejar las cosas como están y en todo caso no parece razonable fundar un criterio desfavorable

si por ejemplo en otras comunidades autónomas españolas las denominaciones de las leyes

y que la presente proposición de ley reciben denominaciones varias de protección de los animales andalucía cantabria cataluña extremadura navarra

asturias de protección de los animales domésticos castilla la mancha y madrid de protección de los animales de compañía castilla león valencia y murcia

en el entorno humano en cautividad galicia de protección de los animales humano islas baleares por lo tanto como verán en relación a los animales de compañía creo que la denominación

en definitiva es el ámbito de aplicación que enmarca la regulación no el título y como les digo el ámbito de la aplicación de la proposición que plantea el grupo popular y

de la normativa vigente son exactamente el mismo otro argumento que nos

oponerse a la toma de consideración dice la iniciativa no supone dotar a la

porque pretende irrumpir en un ámbito en el que la ejecución normativa y gestión administrativa

provocando una distorsión que no es coherente en el ordenamiento jurídico

niveles institucionales nada más alejado de la realidad con carácter general

y gestión administrativa atribuida a los ayuntamientos y las diputaciones forales

de ninguna naturaleza en el sistema de atribución de competencias entre las distintas administraciones ni por supuesto en la coherencia del ordenamiento jurídico

de ley se desprende todo lo contrario la proposición de ley sigue el mismo esquema que la ley vigente en cuanto a la distribución de funciones y gestión administrativa entre las distintas administraciones respeta escrupulosamente lo dispuesto con respecto a estas cuestiones

como el decreto ciento uno del dos mil cuatro también el decreto

la proposición de ley contempla y mantiene las respectivas capacidades o potestades normativas las funciones y la gestión

como de los ayuntamientos dentro de sus respectivas competencias

el control sanitario el registro la identificación de animales con referencia a la habilitación de los veterinarios forales conforme a los requisitos

forales de los respectivos territorios históricos la recogida de animales abandonados la captura de eliminación de cadáveres

los establecimientos de venta las residencias los centros de cría de adiestramiento los centros de recogida y refugio así como las actuaciones de inspección

si bien se aumenta se actualizan los márgenes de los importes de las sanciones

señalar lo he dicho antes pero lo repito que en el ámbito de competencias que mientras la ley actual permite la celebración de competiciones de tiro a pichón

la proposición de ley que hacemos suprime esa función pero no por atribuirla a otra administración simplemente prohíbe dicha práctica en el país vasco completamente

animal de libro en todo caso si hubiese o hubiera algún error alguna disfunción objeción por parte de alguna administración podrá estudiarse podrá repararse modificar la proposición esta proposición es una proposición de ley abierta

etcétera si le dan ustedes paso a que entre en un procedimiento por lo tanto señorías creo que este

el gobierno que la iniciativa no está concebida para dar respuesta específica a la realidad vasca en la medida que aborda determinados problemas

o carruseles y por el contrario no aborda problemas que en nuestra comunidad revisten una importancia relevante como la regulación de concurso de perros pastor hay que decir que el gobierno

de los ayuntamientos donde prohíben algunos de ellos

se prohíba en toda la comunidad autónoma no solo en algunos puntos

parece que el gobierno pretende ridiculizar descalificar o menospreciar la proposición de ley afirmando que no contempla que no da respuesta a la realidad vasca

esto tampoco es cierto la iniciativa no se dedica a abordar el problema

sino que sencillamente es una cuestión que se cita como una más de las veinticinco actuaciones

y que efectivamente son los ayuntamientos los que luego desarrollan las ordenanzas y nosotros lo prohibimos pero se puede quitar si hay una mayoría que dice que no debe aparecer por lo tanto

me parece que es una broma fijarse en esto cuando la proposición de ley

y efectivamente la proposición de ley tampoco aborda el relevante problema de la regulación de los concursos de perro pastor entre otras cosas porque consideramos que no lo debe hacer

que como elemento básico conlleva la utilización de animales domésticos ni la participación de animales domésticos en ferias o en manifestaciones populares todos ellos

específica y se encuentran sujetas a la correspondiente autorización administrativa tanto el gobierno vasco como municipal y lo décimos en el artículo cinco

incumplir la normativa de sanidad y protección animal vigente en los casos de participación de animales en ferias en certámenes

así como no haber obtenido la autorización administrativa exigible para la participación en el correspondiente evento por lo tanto

no sé por qué el gobierno se recrea en este asunto a efectos de la proposición de ley basta con que los poseedores de dichos animales cumplan con las obligaciones

atención veterinaria cuidados y protección e identificación y seguridad establecidos en la proposición y se

los actos señalados como les decía en el artículo cinco de la proposición de singularmente o específicamente

de sustancias o fármacos que puedan causarles daños o sufrimiento con el fin de aumentar el rendimiento en una competición salvo en los casos amparados

un criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley está

incluso si la razón es de carácter político o estratégico

a la verdad ni responden a un análisis detenido y objetivo de la proposición efectuada el gobierno ayer mismo tuvimos conocimiento expreso de su criterio desfavorable a la tramitación de esta proposición

sino por razones puramente políticas porque la proposición de ley la presenta el partido popular porque ayer pudimos comprobar el trato dispensado a la proposición de ley

sobre la oficina anticorrupción con un montón de razones para no tramitar la iniciativa y sin embargo el criterio es favorable no vayamos a molestar al socio presupuestario

de animales abandonados que no fomente suficientemente la tenencia la compra la venta y la cría responsable para luchar contra el abandono y que no apuesta

educativas que fomenten el respeto la protección y la defensa de los animales domésticos o de compañía en general y también está en su perfecto derecho de que mañana llegue aquí otra proposición de ley en términos similares sobre este asunto no aborde los concursos de perro pastor aborde la utilización de animales en atracciones feriales que sea tan integral como esta proposición

y le den el criterio favorable muchas gracias

presidenta señorías el grupo socialista va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley y lo va a hacer fundamentalmente por dos razones la primera por contenido efectivamente tal y como expresa en su criterio desfavorable el gobierno nosotros compartimos esas razones que

explicaciones y ciertamente por compartirlas estamos también en contra porque queremos abordar esta ley esta reforma de la ley del año noventa y tres de una forma mucho más integral pero esta tampoco es la razón fundamental porque la proposición que hace el

perfectamente podría enmendarse y podría resolverse en aquellas cuestiones que nos parezcan adecuadas para darle

en ese criterio desfavorable o que se pudiera apuntar en otras observaciones que cada uno de los grupos quisiera hacer la razón fundamental por la que vamos a votar en contra es y por lo que no vamos a tomar en consideración es por la desconsideración que el grupo popular ha tenido a un trabajo que se viene haciendo durante meses en esta cámara la señora ocariz sabe que nos fuimos de vacaciones con una proposición que se estaba trabajando

y que estaba preparada como digo antes de las vacaciones que perfectamente se podía haber presentado a esta cámara

que no se hizo porque se quiso dar más tiempo a trabajar las observaciones y las propuestas que hicieran los diferentes grupos esto lo sabía la señora ocariz la señora ocariz tenía esa propuesta

arranca del grupo podemos que son ellos los que plantean la iniciativa que la vemos que vamos avanzando vamos dándole el visto bueno y que pretende conseguir a ser posible

la unanimidad de esta cámara pero el trece de septiembre nos encontramos con que no sé si en un gesto

consideración con que se hace esta presentación y esta proposición de ley no nos parece razonable trabajar de esta manera porque quiebra

existir entre nosotros cuando tomamos el compromiso de trabajarla hasta tenerla preparada y poder llevarla por lo tanto como usted comprenderá para cualquier legislación de esta cámara siempre será infinitamente más importante un consenso alto a poder ser

que un trabajo parcial y que una búsqueda de un protagonismo que no era necesario porque el protagonismo no está en qué grupo lo presenta sino el protagonismo está en qué legislación se hace

en qué se da mayor cobertura a la atención de los animales esta es una iniciativa que además venía trabajándose con grupos de fuera de esta cámara hay

de juristas en concreto uno de ellos está reside en el colegio de abogados de bizkaia que también venían haciendo observaciones

avances que se estaban haciendo tanto en la legislación internacional como en la nacional como en las autonómicas y de la mano todos estábamos intentando

alumbrar una mejora de la ley usted ha quebrado ha querido quebrar

este trabajo y obviamente no puede tener una respuesta favorable a nosotros nos parece bien la preocupación de cualquiera de los grupos incluido el suyo por avanzar en este asunto que estamos tratando pero no nos parece bien

utilizar el protagonismo la unilateralidad para abordar esto queremos abordar la relación con los animales con mejores principios

la sociedad evoluciona en ese terreno

el maltrato animal queremos violencia cero en cualquier ámbito de la vida y por lo tanto también aquí queremos el tratamiento ante el abandono ante la identificación o ante las

todo esto a medida que evoluciona la sociedad tiene que tener también su reflejo en las leyes trabajamos en esa dirección por lo tanto como decía queremos trabajar en una legislación integral que esté a la altura de esos avances que ya se han ido produciendo en otros sitios esta es la razón de la

yo creo que usted haría bien en retirar esta proposición de ley creo que haría bien en formar parte lo que puede ser

una unanimidad de esta cámara y yo creo que sería muy bueno para la legislación y también sería muy bueno

que debe de haber en una cámara cuando hay posibilidades de llegar a acuerdos entre todos pero en fin si usted insiste en mantenerse en un cierto nosotros se lo rechazaremos en cualquier caso no puedo acabar esta intervención sin saludar

que comparten techo me dan muchas alegrías

verse citados en un acta de este parlamento muchas gracias eskerrik asko prieto jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza

ohituta egon behar gara y la reflexión que tendríamos que hacer es porque cambiamos una ley

normalmente lo hacemos para avanzar para mejorar así pensamos al menos algunos grupos que nos autodenominamos progresistas pero incluso los grupos que no se

se denominan conservadores pretenden mantener lo que hay aunque sea malo pero nunca empeorarlo y sin embargo para nuestra sorpresa esta ley viene a empeorar lo que ya tenemos es un retroceso respecto a la ley de mil novecientos noventa y tres un retroceso evidente porque solamente va a proteger las mascotas los animales de compañía y no otro tipo de animales como los de renta o producción que ahí han dejado tener tal

y no tenemos más que mirar a qué animales se incluyen en esta ley qué animales en esta proposición de ley qué animales se contemplan para ver el panorama que nos dejaría esta ley yo tengo un amigo un conocido

que él protegería a todos los animales que se pudieran bautizar bautizar en el sentido de darles nombre da igual mimí lulú yoko rambo pero que todo el resto a la cazuela

yo creo que este hombre se sentiría feliz viendo un poco la ley la proposición de ley que ha presentado el grupo popular porque nos incluye

excepto los destinados a alimentación nos incluye las aves excepto las aves de corral para proteger un poco

nos protege los animales acuáticos ornamentales dando por hecho

y nos protegen los invertebrados todos los invertebrados cucarachas hormigas termitas chinches piojos

de compañía que cada cual quiera llevar encima excepto excepto atención

aquí tengo que reconocerles la fina clarividencia que han tenido moluscos y crustáceos

no vaya a ser que se nos estropeen las cigalas los nécoras los centollos los percebes

que podamos tener en la mesa cuando nos invitan a comer gratis y esto es lo que vamos a proteger con esta ley esto es lo que vamos a proteger con esta ley claro

completamente desprotegidos animales como por ejemplo los burros

cargados de cadenas de sogas de cuerdas que les hacen heridas

enfermos a la intemperie sin agua todos esos quedan desprotegidos y estaban protegidos por la ley de mil novecientos noventa y tres tampoco va a proteger

aquellas vaquillas aquellos becerros de menos de sesenta kilos que algunas veces son simplemente de meses que son maltratados en un montón de espectáculos públicos

de esta manera el grupo popular hace una especie de arca de noé de dos velocidades donde tenemos unos animales que van en clase preferente y otros animales que van

van a tener una protección diferente y esto se parece mucho tengo que decir a la forma que tiene el partido popular en hacer política también para los seres humanos también para los seres humanos pero en este caso estamos hablando de animales y hay una cosa que me ha molestado especialmente

que proponen el sacrificio cero y no es cierto sustituyen el sacrificio cero por la eutanasia

una excepción a la eutanasia en situaciones de emergencia o peligrosidad

y ustedes saben o deberían saber que la mayoría de los perros abandonados son perros potencialmente peligrosos

y esos perros en la medida en que se les declare la peligrosidad van a seguir siendo sacrificados con esta ley

lo sustituyen por una eutanasia permitida pero desde luego lo más llamativo de esta ley es

de su nuevo líder nacional de considerar que como españa es va cada vez a ser más grande y más libre va a ser toda igual

pasarla por el corrector de textos y donde pone murcia poner país vasco increíble

desde luego una falta de respeto a esta cámara desde luego no a nuestro grupo pero sí a esta cámara pero claro cuando uno se pone a ver bien esta ley se encuentra con gazapos

el que ustedes mencionen la colombicultura y la colombofilia y por qué no mencionan la caza de gamusinos porque en murcia la colombofilia tiene una tradición desde el siglo catorce tiene un reglamento que la regula y tiene más de cien grupos federados más de cien asociaciones federadas que se dedican a la colombofilia

yo diría que hay más cazadores de gamusinos que colombófilos

cazadores de gamusinos desde luego ha participado en la redacción de esta ley y tengo que decirle además que en la medida que copian sin decoro la ley de murcia no se molestan ni siquiera en cambiar el ámbito competencial

le dan todas las competencias a los ayuntamientos y las que tenían las diputaciones se las pasan a los departamentos del gobierno

alavés que ustedes vacían la diputación alavesa de competencias para dárselas al gobierno vasco para mí completamente sorprendente la manera de meterse en el reparto competencial teniendo en cuenta que tenemos un estatuto de autonomía y una ley de territorios históricos que marcan las competencias de cada institución como digo nuestro grupo no va a

por razones de contenido no nos vamos a meter en otras cuestiones agradezco sin embargo

pero realmente lo que pretendemos en este parlamento es mejorar las cosas mejorar las leyes no se puede aceptar una ley que vaya hacia atrás si no va hacia adelante al menos que se quede como está usted ha dicho

es que lo tenemos que hacer tenemos que hacer porque de lo contrario es ir hacia atrás y eso nuestro grupo no lo va a permitir gracias eskerrik asko becerra jauna erantzunen

becerra señor becerra yo no tengo por qué sumarme a un proyecto que me dicen y me cuentan que están trabajando porque como usted sabe y yo también se lo comenté nosotros también estábamos trabajando eso lo sabe perfectamente no creo que aquí nadie tenga exclusividad para presentar las iniciativas que parece que tiene exclusividad que yo tengo que

porque alguien me cuenta que estoy trabajando todos trabajamos todos trabajamos en los ámbitos a todos nos han venido distintos ámbitos del sector

a explicarnos que hay que modificar esto y cada uno elaboramos un texto en las condiciones que estimamos oportunas que mejoran la ley usted puede hacerse todo el choteo gamusinos vaya a soria que probablemente también haya allí pero de qué me estaba hablando señor becerra que quiere recrearse

me da igual yo presento un trabajo tan respetable como el que dice que usted está haciendo tan respetable desde luego hoy aquí no tenemos nada y entonces como yo estoy trabajando todo el mundo se tiene que parar porque yo que soy preferente ahora en el trato con el gobierno

pero esto de que va y aquí hay cosas que efectivamente se podrán mejorar

cuarenta enmiendas más que artículos qué pasa qué pasa eso sí

lo demás tiene que ser inmaculado y coincidir con su criterio difícil muy difícil

pero lo planteamos algún problema algún problema no hemos vaciado de contenido las diputaciones forales señor becerra le he explicado algún aspecto

porque consideramos que son actuaciones las consideramos como unas prohibiciones o sea

por ejemplo pues sí porque es un maltrato animal de libro

y que hay algunos términos que se pueden mejorar efectivamente pero cuál es el problema

exclusividad para qué para presentar iniciativas aquí oiga un poquito de respeto un poquito de respeto señor prieto

pues si está en su pleno derecho de no admitirlo nosotros hemos hecho un trabajo lo hemos traído

pero con respeto con respeto sin faltar al trabajo de los demás tan digno es mi trabajo como el del señor becerra

que apoyan nuestro trabajo como las asociaciones con las que dicen que están trabajando dicen no lo sé ya veremos y con los mismos criterios y teniendo el mismo

el mismo ámbito de aplicación la ley nuestra que la ley vigente el mismo ámbito otra cosa es que pero cuál es el ámbito de aplicación cuál es el articulado que vale cuál es

el artículo dos y la ley vigente el mismo el mismo no se recree no se recree que no vale

y otra cosa es que se recree y se regodee no vamos a hacer de todos pero el ámbito de aplicación

el artículo dos por lo tanto creo que hay que no y tengo que hacer un argumento

bastante mejorable en cualquier caso eskerrik asko ocariz anderea

señora lópez de ocariz ustedes tienen perfecto derecho a presentar su trabajo si hubieran hecho algún trabajo ustedes lo que se han limitado es a coger la ley de murcia cambiar murcia por país vasco y presentarla es más

recortada y han quitado por ejemplo la cuestión de las colonias felinas que es un asunto que en euskadi está generando graves problemas en muchos sitios hasta el punto de que por falta de regulación

por la forma que tienen de abordar la cuestión de las colonias felinas ustedes no solamente no han hecho ningún trabajo sino que lo que han traído aquí es una ley de murcia recortada si hubieran hecho un trabajo e incluso aunque no lo hayan hecho para mí es perfectamente respetable yo no tengo ninguna exclusividad ni la tengo yo ni la tiene el gobierno por eso estamos aquí por eso ustedes pueden presentar

yo me he limitado a criticar el contenido de esta proposición de ley y no solamente lo hemos hecho los grupos que estamos aquí no solamente lo ha hecho el gobierno a través de un dictamen fíjese la asociación

sin ánimo de lucro de ámbito estatal integrada por profesionales que trabajan en el ámbito del derecho jueces fiscales abogadas procuradoras agentes

y agentes forestales de diversas comunidades autónomas

a través de una nota de prensa del grave menoscabo en la protección jurídico administrativa de los animales en el país vasco que provocaría la proposición de ley

lo que me he limitado a referir en mi intervención le puede haber parecido jocosa yo tenía dos posibilidades de abordar hoy este debate de forma jocosa o con cabreo prefiero hacerlo de forma jocosa por beneficio mío suyo y de toda la cámara gracias

ya no voy a decir si por la izquierda o por la derecha pero desde luego en raya continua en el que se estaba trabajando y se está trabajando en conjunto y tanto se está trabajando en conjunto y se está trabajando bien que a día de hoy tenemos un texto que es bastante más completo y bastante más ajustado a las necesidades

de los animales y a su bienestar en ese sentido

hacer la invitación a seguir participando en esas cosas buenas que también puede estar incluida dentro de su propuesta

ya se está haciendo y entre todos consigamos hacer una renovación una actualización de las leyes

en este caso menos competir y más colaborar que es lo que nos están pidiendo todos los agentes sociales que

este parlamento aprobó la primera ley de protección de animales de euskadi que era y sigue siendo una ley buena y que para la época resultaba avanzada esa ley

aspecto que le ha dotado de más valor y le ha otorgado como hemos visto estabilidad temporal veinticinco años y ahí sigue vigente lo digo además de con cierto orgullo al tiempo que con desasosiego el orgullo es que a mí

de aquel proyecto de ley y representarlo y debatirlo en la ponencia parlamentaria desasosiego porque de eso hace ya mucho tiempo

y por esta alma pero por buena que fuera y sea es probable

nuestra percepción de la protección de los animales lo que significa que es probable que haya que adaptar los textos legales y por tanto no nos parecería mal abordar un nuevo proyecto legislativo ahora bien si la actual ley es tan duradera y la práctica totalidad del mundo habla bien de ella lo lógico sería hacer una nueva partiendo de lo que hasta ahora ha estado vigente

si está bien también lo es porque para cuidar con detalle su contenido en materias competenciales que tienen tanto diputaciones como ayuntamientos

de hecho un alcalde y parlamentario participó en la ponencia parlamentaria de aquella ley lo que hoy nos presenta el grupo popular puede parecer voluntarioso pero se queda corto

ni eudel ni las diputaciones forales han tenido noticias de ella sé que si el anteproyecto fuera aceptado

pero no parece lo más correcto presentar un texto sin aviso o sin negociación previa vuelvo a decir que me pena pero es que desde que se presentó el anteproyecto no hemos tenido

eta inolako azalpenik gabe besteok babestea eskatzea y nuestro voto es no porque no es un texto legal siquiera trabajado aquí en euskadi ya se ha dicho

ahora que está de moda ver lo que copian los políticos unos a otros le hemos sometido a un programa de detección de plagios

nos ha dado que es una copia de una ley aprobada en murcia como ya se ha dicho y hombre con todos mis respetos a murcia nosotros partíamos de una legislación más avanzada

respecto al tema pues seguramente también es notablemente diferente ni mejor ni peor diferente como ejemplo este texto legal que nos ha presentado no cita en ningún momento a lo largo de sus cuarenta y siete artículos y disposiciones transitorias y finales ni una sola vez la palabra departamento

consejería que seguramente se corresponde con la denominación utilizada en murcia pero aquí se utiliza oficial y coloquialmente departamento incluso este proyecto de ley habla en algún momento del colegio oficial de veterinarios del país vasco ente que no existe

sin entrar en más profundidades ni en multitud de defectos del texto derivado de no haber sido redactada pensando en euskadi creo que hay motivos más que suficientes para rechazar este proyecto de ley si además

que llevamos meses negociando un proyecto de ley en esta misma materia impulsado por elkarrekin podemos y que sin previo aviso ni negociación de ningún tipo nos encontramos con un remedo de una ley murciana

de que si en el parlamento que ya de por sí se está convirtiendo en un barrizal se aceptara que se puede sajar

pues es probable que cada tarde saliéramos de esta cámara

por todo ello nuestro grupo ha votado que no a este proyecto de ley lo que no quiere decir

un sí al proyecto que quiere presentar elkarrekin podemos queda trabajo queda negociación y queda nuestra mejor disposición pero aún queda muchas gracias eskerrik asko

legebiltzarkideok bueno ante la iniciativa que traía el grupo eh bildu la señora ugarte pues bueno yo creo que la propia señora ugarte era consciente

que con nuestra coalición iba a ser fácil entenderse porque desde luego cualquier tipo de iniciativa cuyo objetivo y contenidos

a la coalición elkarrekin podemos ha sido tan sencillo que

solo he tenido una conversación telefónica de unos dos o tres minutos y hemos intercambiado un correo electrónico

ante una iniciativa de mejora de condiciones de trabajo de las y los trabajadores en este caso de un sector importante de quienes trabajan en contratas para la administración pública y por lo tanto ahí siempre van a encontrarnos

elkarrekin podemos y además en este caso esta iniciativa también no solo de salir adelante

sino que en nuestra opinión supondría también una mejora de los servicios

la administración pública porque nosotros somos absolutos convencidos y convencidas

a mejores condiciones de trabajo las y los trabajadores desarrollamos mejor también el trabajo donde sí era más difícil

enmienda a la totalidad que presentaron conjuntamente partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi porque aunque era una enmienda pequeñita solo tiene un párrafo

absolutamente extensa para lo que dice y para lo que quiere decir era un párrafo cuatro o cinco líneas que para lo que quieren decir yo creo que con una línea y media era suficiente básicamente lo que le instan al gobierno es a que

a que haga cumplir la ley en relación a los convenios de aplicación faltaría más es que son convenios de aplicación si son convenios de aplicación

a aplicarlos y es triste que haya que pedirle al gobierno que los convenios de aplicación en empresas que están trabajando para la administración pública pues se tienen que cumplir y luego hablaba de la ley a la que ha hecho referencia

que habla de las cláusulas sociales en la contratación pública pues lógicamente se tiene que cumplir por lo tanto era difícil encontrar un punto intermedio entre las dos iniciativas a nosotros nos parece que la contratación

es una de las principales herramientas que tenemos en la administración para garantizar el cumplimiento de los valores

la igualdad la cohesión social etcétera porque supone un porcentaje muy importante de nuestra

en torno a un quince por ciento y por lo tanto nos parece grave que se esté admitiendo y que se esté utilizando también en el caso de nuestra comunidad autónoma una herramienta y por eso nosotros incluíamos el tema de la subcontratación

que se utiliza para degradar las condiciones de trabajo y ahorrar costes y aumentar beneficios de las empresas que es la de la subcontratación esto se hace en el sector privado pero se está haciendo también en las empresas que contratan con la administración pública nosotros pensamos que

en última instancia de la administración pública tienen que estar en el centro es decir y yo lo he dicho también alguna vez

de la legislatura para nosotros la administración pública es también una herramienta puestos de trabajo y para generar buenos puestos de trabajo el objetivo de las administraciones públicas y de los servicios públicos no debe ser solo por supuesto que también pero no debe ser solo generar servicios a la ciudadanía tiene que ser también junto a ello

un sector de empleo público importante que garantice unas condiciones de trabajo dignas por eso nosotros siempre somos favorables a ampliar digamos el funcionariado

una administración pública potente sabemos que aquí hay diferencias ideológicas de fondo con otros grupos

pública puede y debe hacer eso pero también sabemos que la administración pública en determinadas ocasiones tiene que contratar con empresas privadas

la administración pública como contratante debe está obligada a garantizar que todas aquellas personas que trabajen en esas empresas lo hagan

y que evidentemente se puede llevar a la práctica nosotros pensamos que no hay razones para oponerse a ella sin colaborar con esa estrategia que solo persigue maximizar beneficio de empresas

y los trabajadores porque eso es lo que pasa en la realidad la ley de contratación pública además

tres niveles para la contratación en primer lugar debe prevalecer la contratación directa en segundo lugar a través de empresas públicas y en tercer lugar las contrataciones con empresas privadas y subcontrataciones

esto no se respeta en la realidad de euskadi se viene utilizando de manera habitual yo interpelé una vez

se viene utilizando de manera habitual el método de la contratación continua de múltiples servicios que podían ser asumidos

si se desarrollase esta para poder suministrarlos y lo que no puede ser de ningún modo es que esto se aproveche para tener siempre empresas contratadas y que luego subcontratan con condiciones de trabajo

cada vez peores por lo tanto en la iniciativa en la transacción

hemos firmado con el grupo eh bildu hay tres cosas que se pueden llevar a la práctica perfectamente

se puede exigir las condiciones en la que administración pública debe contratar con empresas

no solo que se apliquen los convenios de aplicación porque eso lógicamente lo deben cumplir pero se puede exigir en los pliegos que apliquen los convenios sectoriales los últimos convenios sectoriales porque sabemos que la reforma laboral hizo decaer algunos de ellos cuando antes esos convenios no decaían exigir unos salarios mínimos que se consideren necesarios porque además la legislación europea habla de este tipo de cuestiones porque la contratación pública debe tener también

las cuestiones sociales y desde luego se puede abordar el tema de la subcontratación como no se está abordando en este momento y sabemos

eliminar todas las subcontrataciones que existen pero la práctica habitual de las administraciones públicas y en esto ni la administración autonómica vasca ni las de las diputaciones ni las de los ayuntamientos son excepción la tendencia es siempre ahorrar coste a costa de la mano de obra de las y los trabajadores y esto se puede revertir

no de ley lo que desde luego nos parece que no aporta nada no voy a decir que esté mal pero que no aporta nada es decirle

que cumpla lo que ya son sus obligaciones y además ni siquiera esforzarse en decir cómo lo va a hacer cómo va a hacer el gobierno para

el que traslada por ejemplo la señora artolazabal cuando

yo le referí sobre el fraude que utiliza la patronal con los contratos en práctica y su única respuesta fue que si yo conocía

que lo denunciase en inspección de trabajo se fía todo a inspección de trabajo cuando la administración pública tiene una responsabilidad con eso

y por supuesto la vamos a votar eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak

buenos días egun on guztioi volvemos a debatir hoy en este pleno una proposición no de ley

de este año en la que eh bildu dice que comparte la prioridad que el gobierno vasco tiene para promover el empleo de calidad esa es la base de su proposición y yo he de decirle como ya lo he hecho en otras ocasiones que

y que fíjese si lo compartimos que la incorporamos al acuerdo de gobierno que firmamos con el partido nacionalista para dar sustento

en este parlamento lo saben ustedes hemos debatido en muchas ocasiones y hemos acordado también con ustedes en diversas iniciativas sobre el empleo tanto desde el ámbito público como del privado o desde la perspectiva de generación de empleo y de oportunidades o con motivo de la calidad del empleo a generar

a eh bildu la necesidad de que se realice una subida generalizada de los salarios y hemos instado tanto al gobierno vasco como a los agentes sociales a que sus diferentes ámbitos de competencia acuerden subidas salariales que mejoren las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores vascos

en impulsar el diálogo social en euskadi porque lo consideramos uno de los mejores instrumentos de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores

cuando en las juntas generales de gipuzkoa junto con eh bildu llevamos adelante

y aquí nos irán encontrando en el camino siempre

es que las administraciones públicas lo que deben es garantizar las condiciones laborales que les asisten a los trabajadores y que se les reconoce o en normas legales o en el convenio colectivo

donde fundamentalmente se recogen los derechos que tienen los trabajadores sabe usted que en la nueva ley de contratos del sector público estatal aunque no la ha mencionado ha avanzado también

desde el gobierno vasco cuando se introducen en las contrataciones públicas pues no es otro que garantizar la calidad en el empleo y aunque a usted le parece baladí señor jon el señor sánchez en un principio lo que tenemos es el respeto a las condiciones pactadas entre la patronal

y a usted le parecerá que eso no es nada pero es que hoy en día no se respetan por eso tiene que funcionar la inspección de trabajo y por eso hay que exigir una actitud proactiva de la administración contrata porque sí es cierto que unas buenas condiciones de trabajo lo que hace es tener una calidad de servicios que se han de prestar con una calidad hacia la ciudadanía yo sé que el grupo proponente sabe que me entiende perfectamente lo que le estoy diciendo sabe que en este camino nos encontramos en gipuzkoa nos encontramos en el parlamento vasco y nos acabamos de encontrar también

navarro porque sirva como ejemplo recordarle que hace tan solo cinco meses con los votos del partido socialista se unieron el resto de los grupos que sustentan el gobierno de navarra entre ellos también elkarrekin podemos para aprobar la ley foral de contratos públicos una ley

que en materia laboral iba dirigida a garantizar la calidad del empleo a través de eso que a usted le parece tan sencillo el obligado respeto a los convenios sectoriales estableciendo que serán las retribuciones marcadas en el convenio sectorial

las mínimas a abordar esto es una ley de hace cinco meses pactada por el arco parlamentario que hoy trae aquí esta iniciativa una ley

digo yo que no será un olvido conocen también que entre el registro de su propuesta y el día en que la debatimos en todos estos meses se han producido otros acontecimientos que también son importantes y que también conviene señalar porque el junio del dos mil dieciocho hace escasos meses

algo que tiene valor que es el cuarto acuerdo estatal de negociación colectiva entre la que se ha acordado entre los agentes que tiene que acordarse patronal y representantes de los trabajadores

y que se establezca progresivamente un salario mínimo de convenio

al año con el objetivo del dos mil veinte es decir en términos mensuales están acordando patronal y sindicatos mil ciento sesenta y seis coma sesenta y seis euros sabe

en volver a decirlo creemos y defendemos que es en este ámbito de la negociación colectiva entre los representantes de la clase trabajadora y las empresas en las que se debe negociar y acordar las diferentes condiciones laborales en las que se debe desarrollar

tendrán que hacer llegar a cada uno de los convenios sectoriales en negociación o decaídos un salario

yo no sé si ustedes con esta iniciativa hoy aquí lo que pretender es enmendarle la plana a los sindicatos y decir que mil ciento sesenta y seis coma sesenta y seis para el dos mil veinte no es un salario digno

nosotros vamos salimos del arco parlamentario y nos convertimos en representantes sindicales y décimos mil doscientos mínimo sois unos inútiles bueno pues nosotros no vamos por esa línea

sé que ustedes igual que nosotros lo sabe la señora larraitz ugarte ha intentado aquí decirnos que había alguna sentencia del tribunal supremo y del tribunal superior de justicia pero usted sabe como lo sabe

y le voy a citar textualmente porque fue muy cortito dice no está refiriéndose al gobierno vasco

y es que lo saben ni generalizada ni mínima

el objetivo de esta proposición desde luego mejorar las condiciones de los trabajadores no rellenar

sí hay instrumentos para conseguir un salario mínimo claro que los hay sí por supuesto el primero ya se lo he explicado los convenios colectivos ahí es donde se fijan

pública o privada es que a veces no se cumplen lo mínimo que tendría que hacerse es cumplirse por eso a usted le parece un objetivo menor

el segundo cuál es el segundo para establecer un salario mínimo es el salario mínimo interprofesional algo que seguro le está sonando estos días y que usted dice que le suela como música agradable

son una herramienta potente para contribuir a prevenir la pobreza a fomentar un crecimiento salarial más dinámico y cuando nos presentamos a las elecciones en el dos mil quince y en el dos mil dieciséis lo hicimos con una propuesta de llegar progresivamente a un salario mínimo de mil euros al mes en catorce pagas

dentro de la administración general del estado para fijar el salario mínimo interprofesional porque creemos y creo que lo compartimos con todos ustedes de que el salario debe garantizar un nivel de vida

esta es la segunda vía esta es y no es otra y en ella es en la que se marca el acuerdo alcanzado con podemos para fijar el salario mínimo interprofesional para el próximo año para el dos mil diecinueve en novecientos euros al mes algo que parece que parece que puede no tener impacto económico pero que tiene un impacto económico previsto de trescientos cuarenta millónes de euros

inmejorable para que esto que yo le acabo de contar del salario mínimo interprofesional de novecientos euros esa música que a usted le resulta agradable con sus dos votos en el congreso de los diputados

las condiciones de las y los trabajadores es una mejora que no se pretende solamente con el salario mínimo interprofesional porque en ese acuerdo parlamentario como conocerá también

en la materia de negociación colectiva para qué para regular una ampliación del régimen de no caducidad de los convenios colectivos y para también acabar con la reforma

a garantizar la igualdad de condiciones en subcontratación señora ugarte desde esa tribuna desde la tribuna del congreso de los diputados con esos votos con los votos que ustedes tienen en el congreso de los diputados y no en esta cámara ni con los votos de esta cámara

y de precariedad en la que hoy se encuentran los trabajadores desde ahí señores de eh bildu y no desde aquí por eso yo lo que les emplazo es a que sean útiles allí donde pueden apoyen esas medidas que dicen aquí

que no tenga un objetivo concreto lo tiene y es que se respeten los convenios sectoriales vigentes que sean de aplicación no podemos establecer

de competencia pero sí que es cierto que si ellos acuerdan un convenio colectivo eso tiene que ser como digo yo sagrado para el cumplimiento de las contrataciones tanto públicas

un salario mínimo de mil doscientos euros solo en las contrataciones públicas de euskadi

solo en las contrataciones públicas y a través de las mismas al margen de lo que puedan decir los convenios colectivos porque ustedes dicen y en cualquier caso

lo que puedan decir los convenios las mesas de negociación y además ustedes determinan cuál tiene que ser el convenio de aplicación todo ello entendemos

que sin haber hecho una valoración con la responsabilidad debida sin haber valorado debidamente todas las implicaciones que estas medidas que proponen pueden tener principalmente en la realidad socioeconómica de este país pero principalmente en los

por la contratación pública así desde el punto de vista jurídico su iniciativa está abocada al fracaso porque implica la modificación de la legislación laboral

no está en euskadi tampoco está en euskadi la posibilidad de revertir una reforma laboral por ejemplo la operada en el dos mil doce que puede que no nos guste que no nos gusta de hecho pero no tenemos capacidad de revertirla en este parlamento

no piden en madrid lo que piden aquí no piden en madrid donde está la competencia lo que piden aquí en euskadi que no la tenemos saben

no es posible jurídicamente no es posible con el marco legal

por un lado determinan cuál tiene que ser el convenio independientemente de lo que diga la normativa alteran la prelación de fuentes de la normativa y por otro lado

un salario mínimo ni la contratación pública tiene competencia para establecer

que la contratación pública no tiene competencia para establecer para obligar a un salario mínimo no la tiene y por otro lado

hay que hacerlo a nivel general y eso es a través de la legislación laboral por lo tanto no se pueden hacer trampas no se pueden utilizar puertas de atrás

el derecho comunitario y la jurisprudencia europea en concreto incluso la directiva veinticuatro sobre contratación esa misma directiva que es sobre contratación

la contratación no es competente para establecer un salario mínimo nos guste o no nos guste esto es así esto no son escusas ez dira aitzakiak

y nosotros desde luego nos movemos nos movemos en la realidad deseos tenemos todos eso sería aitzakia deseos tenemos todos pero desde luego nosotros

en la realidad y usted nombra como referente la norma foral de gipuzkoa que incluía

yo sabía que usted iba a nombrar también la norma foral de gipuzkoa y realmente si

del país vasco y el tribunal supremo creo que vienen a decir lo mismo

dicen lo mismo y usted y usted lo sabe y desde luego como le ha dicho al portavoz del partido socialista esa norma foral tampoco establecía un salario mínimo y si no lo hacía sería por algo ustedes

quieren introducirlo aquí nosotros

contrataciones públicas se pueden desarrollar muchas políticas sociales dentro del estrecho margen que le deja

el gobierno vasco hace años ya inició el camino y está avanzando y este parlamento en esa misma línea aprobó esa ley que usted sabía que yo iba a nombrar tres barra dos mil dieciséis de siete de abril para inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública pero desde luego eso esa posibilidad de incluir cláusulas sociales no es lo que ustedes están pidiendo aquí

excede de nuestro ámbito competencial y eso no son excusas eso es una realidad

porque también yo no sé si ustedes donde gobiernan actualmente van a imponer van a imponer estas medidas concretas que piden hoy aquí

exigir en todas las contrataciones públicas un salario mínimo

andaría actuaria con más responsabilidad

va a ser en contra principalmente por las razones jurídicas expuestas pero también encontramos razones en el ámbito social

suficientemente no han valorado especialmente la implicación que la aplicación de estas medidas pudiera tener en todos los miles que dicen ustedes miles de puestos de trabajo que están afectados por la contratación pública y por otro lado

si esto es lo óptimo si esto es lo deseado o lo adecuado no sé por qué no lo piden para todo el mercado laboral no sé por qué se ciñen

de hacerlo abogaríamos por abarcar todo el mercado laboral y también estamos de acuerdo en que se mejoren los salarios y las

abogamos por el empleo digno y de calidad es una de las premisas de este gobierno y de este grupo parlamentario pero las cosas hay que hacerlas con responsabilidad y ustedes quieren dar una imagen distorsionada

sujetándose a la legalidad y se preocupa y ocupa de las condiciones laborales de los y las trabajadoras sean medios propios o sean trabajadoras

de empresas y así entendemos nosotros la ejemplaridad que ustedes que ustedes exigen

por otro lado en cuanto a la subcontratación nos alegramos que finalmente la propuesta de elkarrekin podemos de eliminar inicialmente pedían eliminar la subcontratación

nos alegramos que haya dominado la sensatez y por lo menos se haya eliminado

pero reducirlo al máximo y nosotros entendemos que la subcontratación

que es una característica esencial de este país

esta proposición esta iniciativa en febrero hace ocho meses y de repente la traen la traen ahora ocho meses después

vimos la inclusión en el pleno nos preguntamos cuál sería el motivo de traerla ahora

con el acuerdo que en madrid han adoptado hace quince días podemos y el partido socialista donde acuerdan

que ese es el motivo real de traer esta iniciativa hoy aquí y en ese aspecto no podemos obviar que nos sorprende la postura de elkarrekin podemos en madrid podemos ha firmado hace quince días novecientos euros y hoy aquí

pide novecientos euros la verdad que entendemos que algo

de la iniciativa no es su literalidad sino traer un texto fácil un titular fácil y que sabían que nuestra respuesta iba a ser

no por un capricho no porque no puede ser en este momento aquí ni en este momento no por el modo no porque no se puede hacer a través de una proposición no de ley y no porque este no es el foro sin perjuicio de otras razones socioeconómicas

en otras instituciones para hacer valer sus pretensiones y nosotros así hemos presentado en nuestra enmienda que defendemos

en la cual nos remitimos a los convenios como no puede ser de otra forma y ya la ley tres barra dos mil dieciséis de inclusión

de cláusulas sociales como tampoco puede ser de otra forma así defendemos la misma

por lo tanto nosotros votaremos únicamente a favor de nuestra enmienda

de la transaccional y les animamos también a replantear su postura porque realmente lo sensato sería solo aprobar la nuestra eskerrik asko eskerrik asko larrauri

muchas gracias señora presidenta señor consejero señorías buenos días a todos

en su primera intervención nos está haciendo una pequeña trampa y se lo digo con todo el cariño si me permite esa expresión

al comienzo de su discurso que ustedes abogan por un empleo de calidad con unas condiciones económicas dignas para todos los trabajadores bien sea del sector público bien sea del sector privado y que todos aquellos que no estén conforme con esa petición pondrán escusas legales o escusas pláticas para no sacar adelante la proposición que usted nos trae hoy

porque ese empleo sea un empleo de calidad y porque dentro de las condiciones de calidad de ese empleo especialmente los salarios sean dignos para que cada trabajador pueda llevar a cabo su proyecto de vida personal en las circunstancias que considere oportunas eso es algo por los que todos los que estamos aquí y los que no

están perfectamente de acuerdo ahora bien si para eso lo que hay que hacer es apoyar una proposición que usted nos trae

a debate que ya presentaron hace mucho tiempo que desde mi punto de vista es ilegal pues entonces nosotros no podemos apoyarla y no quiere decir que no compartamos el objetivo inicial que usted pone encima de la mesa que era el primer párrafo de esa

usted dice que es una propuesta legal yo permítame que se lo diga lo dudo bastante

para todos aquellos que trabajen en puestos derivados de cualquier contratación de la administración incide en distintos aspectos jurídicos de las relaciones entre empresa y trabajadores que creo que se escapan del ámbito competencial de este parlamento y por supuesto del ámbito competencial del gobierno

empresa y trabajadores perfectamente reguladas por sus convenios colectivos y yo entiendo que nosotros no podemos obligar a ninguna empresa

y trabajadores dentro de los límites que ellos han considerado

pero imagínese que estamos dentro de empresas que trabajan para el sector público y que prestan servicios también para el sector privado aquellos trabajadores que durante determinados días de la semana presten servicio en la empresa privada tienen que tener también ese

o solamente los días que presten sus servicios para empresas públicas no tiene mucho sentido ha mejorado mucho

la enmienda de podemos porque ya por lo menos nos habla de tres niveles competenciales el del gobierno vasco el de las diputaciones y el de los ayuntamientos todas las administraciones públicas de la comunidad porque es que nos veíamos en una situación muy curiosa yo estaba pensado en concreto en una empresa en álava

trabaja fundamentalmente para las administraciones públicas trabaja para concejos trabaja para ayuntamientos trabaja para diputación foral de álava

si aprobamos esto aquí con su texto inicial solamente afectaría a los contratos que provienen para esa empresa

porque usted nos pone el ejemplo encima de la mesa de estos trabajadores de tabakalera que cobran mil euros y que en esas condiciones no se puede vivir en san sebastián con mil doscientos euros se puede vivir en san sebastián

por qué no mil ochocientos por qué somos tan cicateros por qué ponemos el nivel tan bajo o por qué lo ponemos

la patronal y los sindicatos de implantación nacional de llegar a esos prácticamente unocero unosetecientos euros en el año dos mil veinte

sinceramente y me va a permitir que se lo diga me parece una simple ocurrencia

incidía sobre la relación entre los empresarios y los trabajadores a través de

no es un ámbito en el que nosotros debamos meternos pero también incide en la normativa de toda la contratación pública que no es que sea una normativa estatal que ya sé que discutir con ustedes sobre lo que es normativa estatal no es normativa estatal

y que lo que quieren es la propia ya pero es que tenemos la estatal y yo creo que en la normativa estatal de todos los contratos del sector público mire usted que es diversa y prolija y complicada esa normativa yo no veo encaje a colocar

euros por cierto mil doscientos euros que no especifica porque si generalmente en los convenios hablamos de catorce pagas en este caso estamos de doce pagas o de catorce pagas

se hace la referencia al mismo a través del salario diario para que no haya ningún tipo de equívoco ahora está en veinticuatro coma cinco o veinticuatro coma siete euros diarios pretenden con un pacto propagandístico que tampoco aclara exactamente los términos porque no los recoge elevarlo a treinta y usted pide que sea a cuarenta pero depende cómo leamos

euros prácticamente no nos concreta nada no se basa absolutamente en nada hacer la propuesta que nos hace y pretende que rompamos las relaciones entre empresarios y trabajadores a través de los convenios que rompamos la normativa estatal de

del sector público que igual esa tampoco nos vale porque tenemos que hacer una propia no lo sé me parece un poco locura

en el salario mínimo interprofesional salario mínimo interprofesional que usted ya está diferenciando porque usted nos habla solo para aquellos que trabajen para el sector público

tendríamos dos salarios mínimos interprofesionales uno para el sector privado y otro para aquellos que trabajan del sector público caray eso es crear unas diferencias entre los trabajadores

se lo digo sinceramente vuelvo al ejemplo que le he puesto de este centro especial de empleo de los trabajadores que trabajan para el sector público en labores de jardinería

en función del trabajador a qué se dedique y cuántas horas dedique bien sea para un contratante público

para las residencias de tercera edad forales en esos casos

los de los trabajos forales no los que trabajan para las residencias municipales esos tampoco tienen por qué tener

de una empresa con número determinado de trabajadores que lo que hace es prestar servicios

y cuando trabajen para empresas privadas dentro de esa misma lavandería para hoteles por ejemplo los que hacen el turno de limpieza de determinados hoteles

condiciones económicas que usted solamente pide para el sector público me parece un poco irreal y absolutamente injusto porque crearía muchísimas diferencias dentro de una misma empresa en función de cuál sea el puesto de trabajo que están realizando

aguantar ese tirón que usted está proponiendo o sea realmente la diferencia entre aquellas empresas que partamos que están con un

todo eso es una ganancia íntegra que se queda dentro de la empresa yo sinceramente pienso que no

pero nada más lejos de la realidad usted cree que realmente

de setecientos treinta y cinco euros cuando pueden pagarle los mil doscientos euros brutos

pues no sinceramente yo no creo en ese modelo empresarial y por eso

popular vamos a votar que no algo que por otra parte usted ya debía suponer porque ni siquiera nos ha llamado para intentar llegar a un acuerdo o para animarnos a que suscribiéramos en la votación final el acuerdo al que ha llegado mejorando en mucho su

y porque entendemos además que está volcándole una responsabilidad al gobierno que ellos dentro de sus competencias no pueden asumir

si esta medida es legal por qué nos trae una pnl porque no nos trae una proposición de ley para

para obligar al gobierno a que lleve a cabo lo que usted está pretendiendo con su iniciativa lo digo porque eso si nos daría
tiempo para un debate mucho más sosegado mucho más técnico mucho más jurídico muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

es un órgano legislativo entonces en los órganos legislativos yo entiendo que hay que hacerse los deberes y que hay que aprender un poco de leyes de jurisprudencia mirar lo que es posible y lo que no es posible entonces para que cojan unos pequeños apuntes vale artículo cuatro punto dos

dice que en los pliegos de clausulas administrativas particulares de los contratos se incluirá el siguiente contenido que este contrato se haya sujeto al complimiento de disposiciones legales etcétera etcétera

y obras públicas de gizpuzkoa publicado en el boletín oficial de gipuzkoa esto ha sido refrendado por

y por el tribunal supremo en el dos mil dieciséis este artículo el cuatro punto dos está en vigor está en vigor y léase la sentencia porque yo la leí ayer mismo otra vez por si acaso por si me equivocaba está en vigor esto quiere decir que esto es legal esto quiere decir que esto es legal y con todo el cariño le voy decir que creo que usted se ha preocupado un poco más de analizar

sabía que no le iba a aprobar después de todo el desaguisado que han hecho con las cuestiones laborales en el estado español hasteko

pilota beste alde batetara botaztea es que lo que aquí pasa es que todos estamos a favor del empleo digno porque no se puede decir que estamos en contra del empleo digno

otra cosa es garantizarlo como decía alexia garantizarlo qué mecanismos tiene le ley tres barra dos mil dieciséis para garantizar que eso se hace así porque si eso estuviera garantizado

en tabakalera los trabajadores no huirían no se quejarían no habría huelgas y casi prácticamente la totalidad de la subcontratación en la administración pública está de huelga y está de huelga porque no tiene salarios dignos iruditzen zait hau

perfectamente que se aprueban por decisión del consejo de gobierno y no necesitan nuestros votos en el congreso eso no se debate en el congreso no otra cosa es

anualmente todos los eneros el consejo de gobierno por tanto tranpak egitea

podemos discutir de hasta dónde podemos llegar dentro de los márgenes legales pero lo que a mí no deja de sorprenderme es que cada vez hablamos de condiciones de trabajo se use como justificación y se diga en este caso por parte de la señora castelo que es recurrente con esto aunque hoy desde luego también el señor ruiz de arbulo también

se diga que lo que se pretende es sustituir a los sindicatos cuando saben ustedes además que esto no es verdad esto es un parlamento esto es un parlamento

y los derechos de los trabajadores son también cuestiones políticas y lo que vayamos a acordar aquí nunca

los convenios colectivos que acuerden trabajadores

no van a poder los convenios establecen condiciones mínimas establecen condiciones mínimas y hoy estábamos hablando de condiciones de trabajo de empresa que contratan para la administración pública

la administración pública puede ejercer la responsabilidad que tiene sobre puestos de trabajo que dependen de ella en última instancia de eso es de lo que estamos hablando y podremos

desde hasta dónde nos deja o no nos deja la legalidad

que a quienes han traído en esta ocasión la propuesta no les ha llegado ninguna contraoferta sobre esa cuestión y se pone el foco

euros nosotros incluíamos en nuestra enmienda la cuestión de las subcontrataciones porque nos parece fundamental porque nos parece importante porque es absolutamente legal y se puede hacer la administración

una política no es que pueda combatir es que puede tener una política diferente a la que se está haciendo no solo la administración vasca todas las administraciones de nuestro entorno ese es el modelo es un modelo que se da en el ámbito privado y que del ámbito privado también las administraciones públicas han copiado es

órganos del capital internacional es abaratar costes a base de abaratar la mano y para eso se utilizan las contratas y las subcontratas se desarrolla por parte de la administración pública como yo decía como he dicho muchas veces un sector potente para garantizar las necesidades que como administración pública tenemos

en las contrataciones que se hacen se hace un abuso de este método y además no solo no es contrario a ley

ley para la contratación pública como he dicho antes establece una serie de prioridades a la hora de contratar y esas prioridades no se cumplen y en euskadi no

contrataciones de empresa para todo tipo de servicios que se pueda a pesar de haber también acuerdos con los sindicatos que los sindicatos han denunciado muchas veces que no se cumplen y que este gobierno reiteradamente insiste en decir que sí por eso también duele oír que se utilice a los sindicatos de excusa en esta cámara cuando algún grupo parlamentario

de trabajo cuando luego constantemente a los sindicatos cuando vienen a decir que no se cumplen acuerdos con los gobiernos se les niega la mayor

iniciativa es realmente posible se puede llevar a la práctica las cuestiones sociales tienen que estar en la contratación pública hoy en día el único criterio que se maneja

a pesar de existir cláusulas sociales a pesar de existir esa ley vasca relativa a las cláusulas sociales y la normativa europea también lo prevé

que contar con este tipo de cuestiones con las que no se cuentan y hoy no estábamos aquí hablando de salario mínimo

que efectivamente claro que no hoy no estamos hablando del salario mínimo interprofesional que efectivamente no tenemos competencias para establecer salario mínimo interprofesional

en la administración pública para los contratos de trabajo que dependen de la administración pública para trabajadores que trabajan para su empresa privada

de todos y eso se puede hacer y sí defendemos aquí lo mismo que defendemos en otros sitios en cada sitio habrá unos niveles de vida necesarios y unos salarios diferentes no es lo mismo vivir en donosti que vivir en otras partes del estado

de este estilo en otras partes del estado y en otros sitios hemos hablado de mil

defendemos exactamente lo mismo y hemos llegado a un acuerdo no podemos sino unidos podemos donde está también izquierda unida hemos llegado a un acuerdo presupuestario para un salario mínimo de novecientos euros

a la señora ugarte que es una mejora
para muchísima gente en el conjunto del estado amaitzen joan acabo ya señora presidenta

con este tipo de iniciativas que en euskadi pueden mejorar la vida de las y los trabajadores de nuestra comunidad eskerrik asko hernández jauna

porque aquí la única novedad que tiene la proposición no

ugarte que esto es una cámara legislativa y usted puede traer tranquilamente sin ningún problema una proposición de ley

para el tema de cláusulas sociales la pueden traer si tan interesada esta en realmente tener un trabajo serio parlamentario tráigala elkarrekin podemos la ha traído pero la ha dejado también como ustedes desde febrero en el cajón ya veremos cuando lo quieren activar quiero decir trabajo serio todos en fin no vale salir aquí a la tribuna y a venir a decir y aquí de lo que estamos hablando

nuestro presidente de gobierno saque adelante unos presupuestos que son necesarios para el consejo de gobierno aprueben los novecientos euros de salario mínimo interprofesional porque claro los trescientos cuarenta millónes de algún lado lo tenemos que sacar

y ahí necesitamos no solo sus votos también voy a intentar solicitar los votos del partido nacionalista vasco como no puede ser más de otra forma porque los de

línea de todas formas es difícil encontrarse con nosotros se lo digo tanto al señor hernández como a la señora ugarte porque a mí no se ha dirigido nadie

o el defecto digan ustedes lo que quieran de que piensan que hablando con el portavoz del grupo nacionalista vasco están ustedes hablando con el partido socialista y están ustedes muy equivocados había facilidad o no de llegar a un acuerdo pues es que ni lo hemos explorado de todas formas es fácil que ustedes dos se encuentren aquí

guipuzcoana que lo que le ha dicho a usted el tribunal supremo es y tiene valor

del convenio sectorial más cercano vigente o que haya sido publicado en el boletín o sea iban a unas especie como de ultraactividad a una defensa de ultraactividad eso es lo que le ha dicho lo que no le ha dicho

no se lo ha dicho no engañe no falsee eso es lo que ha dicho lo que ha dicho es convenio sí y a quién le corresponde es decir no tendrían ese problema en gipuzkoa tampoco se preocupe es decir si la norma guipuzcoana no tenía que decirlo porque el convenio de gipuzkoa no tienen ningún salario por debajo de mil doscientos euros al mes

por qué lo que se ha puesto es el respeto al convenio colectivo y yo ya sé que usted dice que yo soy muy reiterativa diciendo aquí que no hay que sustituir

su función pero es que usted lo que me está diciendo es que si una empresa una empresa responsable

cumple el acuerdo con los sindicatos pues no es suficiente viene usted aquí sale enmienda la plana a los sindicatos

pues por eso vas a cobrar mil cincuenta pero como limpias también la de al lado

imagínate de una sociedad de rehabilitación pública que eso nos pasa a nosotros por ejemplo en mi municipio entonces vas a cobrar mil doscientos pues hombre esto es lo que estamos intentando es un salario mínimo interprofesional

para otros eso es nuestra competencia no sabe dónde está la mejora de condiciones laborales para los trabajadores competencia de los políticos mire en el congreso de los diputados y sabe usted cómo aprobando un salario mínimo interprofesional más alto sabe usted cómo derogando la reforma

sabe usted cómo terminando la reforma del artículo cuarenta y dos del estatuto de los trabajadores para garantizar en subcontratación igualdad de condiciones para eso también necesitamos sus votos y los suyos

que estamos aquí es fácil venir y rellenar pero tampoco se puede ni falsear me decía hay que ser coherente lo somos no se tiene que mover usted de posición no me he movido pero no vengo a engañar a nadie yo sé perfectamente que mil doscientos euros de primeras no es nuestra competencia

unidos podemos podemos o izquierda unida o eh bildu

del salario mínimo de mil doscientos y me sorprende más cuando ha dicho que ya sabían que es que no tenemos competencia pero bueno

poco rigor cuando menos y señora ugarte y señor hernández yo me reitero

en que esto que piden no es posible que no tenemos competencias que esto que piden en su proposición no de ley no es posible

se impone a los deseos que tampoco tenemos competencia para revertir la reforma laboral por lo tanto no hagan trampas no hagan trampas no hagan trampas ustedes nosotros no ponemos escusas pero ustedes no hagan trampas y no engañen a la ciudadanía no intenten confundir a la ciudadanía con un titular de mil doscientos euros en las contrataciones públicas en euskadi y que no ha salido porque

no es posible no es posible jurídicamente exigirle eso al gobierno vasco no es posible y usted lo sabe y por otro lado las consecuencias y también ha hablado de la ley de contratos que la ley de contratos fomenta la introducción de clausulas sociales claro claro

es no permite que se pueda obligar imponer un salario mínimo no no permite eso fomentar las cláusulas sociales sí y eso es lo que permite

que traspone la directiva europea pero no permite hacer lo que ustedes quieren hacer a través de esta proposición de ley no lo permite y por otro lado las dudas sociales también son

en la situación que podrían quedar que podría quedar en la pequeña y mediana empresa de este país y por eso

si el gobierno vasco decidiera introducir esto en sus contrataciones toda la contratación de gobierno

habría riesgo de impugnaciones de recursos y ustedes y una vez que esos recursos que esos servicios y esas obras no funcionaran correctamente

que eso no funciona bien actúen con responsabilidad y vosotros con esta solo para las contrataciones públicas están creando trabajadores

los trabajadores de una empresa que trabaja para la contratación pública y que los que trabajan

y de segunda y eso muy de izquierdas y muy de la gente muy popular no me parece por otro lado las subcontrataciones me alegro que no se hayan eliminado que no propongan eliminarlas porque efectivamente es

ha vuelto a hablar de gipuzkoa dicen que hicieron claro que hicieron

tanto la sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco y del tribunal supremo no anula esa norma comparto pero es que le dieron en la línea de flotación de esa norma usted si nos leemos las sentencias yo me las leo sé que usted también pero yo también me las leo y la sentencia dice que lo que quiere decir

son ambas sentencias interpretativas que dicen que es que la norma foral cuando decía tal en ese artículo cuatro punto dos que dice lo que quiere decir es que hay una remisión a la legislación laboral que es lo que

en toda mi primera intervención que hay que remitirse a la legislación laboral tanto para convenios como para imponer un salario mínimo y le repito que tampoco pusieron

que es que su norma foral hoy en día dice lo que dice no lo que usted dice que dice y euskadi efectivamente no es competente yo tengo clara la función de este de este parlamento yo no sé si usted la tiene y por otro lado

y lo de los novecientos euros firmados hace quince días en madrid y hoy aquí

no consigo entenderlo usted habla de los niveles de vida de cada sitio y yo no lo consigo entender antes de que entre en vigor

del su secretario general yo no sé si no le pidieron en madrid consejo a usted

los novecientos euros era por debajo de los novecientos euros era donde

ustedes me confunden y nos confunden y que me confundan a mí no pasa nada pero confundir a la ciudadanía eso es más grave y por tanto

que actúen con responsabilidad que nosotros como siempre actuamos con responsabilidad y esperemos que ustedes también lo hagan eskerrik asko eskerrik asko

entendía que nos estaba tratando de hacer trampas con un discurso envolvente en esta segunda intervención lo que voy a darle es la enhorabuena y la bienvenida al estado de derecho

que está de acuerdo con las sentencias que elabora el tribunal supremo sobre cualquier materia supongo que será en general o igual es solamente sobre las normas forales que ustedes hicieron en su época de gobierno

efectivamente está de acuerdo con el sistema de derecho que nos permite estar en esta tribuna y hablar de lo que estamos hablando bienvenida de nuevo a usted y a sus compañeros sí comparten esa posición por supuesto que sí

foral muy concreta del territorio histórico de gipuzkoa que no es extrapolable a la realidad que estamos hablando y además

de que se debe respetar los acuerdos entre empresa y trabajadores que son cosas completamente distintas yo le he dicho que incidía

que de eso no habla para nada la sentencia la libertad de pacto

empresa y trabajadores no la labor de los sindicatos y en tercer lugar la normativa impregnada por la normativa europea de la contratación del sector público y de eso la sentencia

proposiciones de ley que podamos debatir aquí y que podamos aplicar si usted lo tiene tan claro pero yo desde luego y me va a permitir que de momento mantenga mis dudas en el primer turno

de la enmienda conjunta que han planteado el partido socialista y el partido nacionalista vasco que nosotros tampoco vamos a poder apoyar

pero no nos ponen ningún ejemplo encima de la mesa de que no las estén cumpliendo

que procuran hacer habitualmente que lo hacen sin que nosotros se lo tengamos que recordar

cuando se ha probado que no se estén cumpliendo la normativa tanto de respeto

agradezco profundamente que en sus minutos de publicidad y labor comercial no haya pedido nuestros votos en el congreso de los diputados para los próximos presupuestos generales del estado porque me habría puesto en un compromiso al tener que decirle que no muchas gracias

parlamentarias voy a tocar algunas reflexiones que hemos hecho en elkarrekin podemos sobre el caso margüello tres de los cuatro acusados en el caso margüello no irán a la cárcel pero serán castigados con penas entre siete y nueve años de inhabilitación administrativa para el ejercicio de cargos públicos

ha habido amiguismo corrupción y malversación de fondos públicos el gobierno vasco ha tenido una oportunidad de demostrar un sentido ético en la acción política y de prestigiar

ha perdido esa oportunidad yo no voy a ser largo ha habido tiempo para hablar

solamente voy hacer una pequeña introducción y dos breves

sencillas después de diez años de que el gobierno vasco que dirigía el partido socialista

en beneficio de las empresas vinculadas al ex jefe de sanidad del hospital de cruces

dos de ellos altos cargos partido nacionalista vasco de los delitos más graves a los que se enfrentaban fraude malversación de caudales públicos

que es la cantidad de dinero que recibieron las empresas de margüello en esos contratos

durante diez años el ministerio fiscal destacaba que las empresas de margüello no aportaban nada eran solo intermediarias

ustedes no lo llamen malversación de fondos si no quieren pero realmente es un tema grave que tendremos que reflexionar en la estrategia de colaboración en el mundo sanitario público privado y por otra parte todos los que trabajábamos en el departamento de salud en aquellos años estoy hablando del periodo dos mil cuatro dos mil siete sabíamos

el departamento de sanidad en los últimos quince años las tasas de ganancias

eran las más altas nos sorprendió lo hablábamos en el café los inspectores médicos nos sorprendió esa tasa de ganancia que no ha aparecido

dos mil cuatro dos mil siete casi diez años donde las empresas de margüello que no aportaban nada

para las listas de espera que había que disminuir

jon darpón que actualmente es consejero esta situación es bastante difícil de entender si no partimos de dos supuestos que los hemos vivido directamente

exconsejero de salud del partido nacionalista vasco durante ocho años y juan carlos margüello

eran amigos eran amigos desde la facultad eran amigos personales

eran amigos y el segundo supuesto el modelo de gestión planificación y dirección del departamento de salud y sus tres delegaciones territoriales

estaba basado en mutuas lealtades y complicidades en toda su estructura no se puede entender todo lo que ha pasado

la amistad entre el exconsejero y juan carlos margüello y una toma de decisiones una cultura de toma de decisiones autoritaria y vertical

incluso el exconsejero forzó un documento de adhesión

se estaban vertiendo sin pruebas que firmaron todos los altos cargos algunos

se les dijo que firmasen ese documento incluyendo nuestro consejero jon darpón pruebas las pruebas sobraban como conoció exhaustivamente la comisión de investigación que este parlamento

laura garrido por esa comisión de investigación pasaron decenas de personas técnicos responsables que conocieron los hechos

pedimos investigar hasta sus últimas consecuencias y devolver el dinero utilizado con malas artes de la administración pública dice entre otras cosas el dictamen de esta comisión

casi doce años para la sentencia es normal que un juicio dure doce años dos gobiernos cambios en la opinión fiscal este era un tema de confrontación del pnv y del psoe esto era un delito

dos reflexiones y acabo una reflexión necesariamente de carácter político hay que hacer caso al parlamento

delante de la ciudadanía lo que hacemos lo que décimos en las comisiones en los plenos en las comisiones de investigación en las proposiciones no de ley

como capacidad de control político legislativo esta es la primera reflexión política no hacer caso al parlamento y a sus distintas mayorías que en este caso comisión tras comisión ha tenido

nuestra capacidad política como institución el gobierno pues debe prestigiar la sanidad pública vasca como objetivo fundamental la educación pública las pensiones públicas las políticas sociales públicas no autorizar chapuzas

lo público siempre pierde cuando compite con lo privado porque es una competencia desleal siempre pierde porque se descapitaliza

el trozo de tarta que no va a lo público y va a lo privado no lo va a lo público si es muy sencillo de entender se descapitaliza cuando juanjo ibarretxe exlehendakari dijo

se invierta en el servicio público y en aquellas unidades de servicios técnicas

de disminuir las listas de espera porque no eran

eran estructurales el gobierno debe dar ejemplo de buen hacer de buena gobernanza

y la segunda reflexión es una reflexión de tipo ético la ética estudia lo correcto o equivocado del comportamiento humano

un observador independiente de cualquier ciudad de nuestra tierra qué ha observado en todo el proceso

modifican su comportamiento ante quebranto de las mismas leyes de forma evidente segundo que lo importante no es la ley sino si perteneces o no al grupo de poder político dominante tercero que no importa la opinión del parlamento

sino lo que importa es la opinión desnuda del partido político hegemónico en el gobierno y que por lo tanto desde el respeto a la independencia judicial esto delante de la ciudadanía pone entredicho la independencia al menos de las opiniones de los fiscales

porque yo solamente quería trasladar estas reflexiones sencillas esto no ha acabado bien

más que obvio la pérdida de oportunidad ante una corrupción obvia del gobierno vasco ha sido obvia y

ante la corrupción el amiguismo el quebranto de la ley y la soberbia política exigimos que se cumplan con las recomendaciones de la comisión de investigación parlamentaria no es otra cosa no quiero insultar a nadie no quiero plantear aquí se ha hablado mucho de margüello está claro para todos ustedes

no debe perder oportunidades políticas de prestigiar su propia acción

de los gritos que escuchábamos del doctor elorriaga en el departamento de salud

gritos coléricos era espectacular lo discutíamos todos los días

laura garrido del partido popular natalia rojo del partido socialista porque hemos llegado a una transacción que

pero plantea cuestiones básicas de devolver la soberanía a este parlamenta e intentar trabajar con cierta ética algunos aspectos del trabajo hemos dejado pelos en la gatera

agradecer este comportamiento a los grupos políticos para llegar a una transacción de mayoría pues es de agradecer eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

prevaricación al señor margüello antiguo jefe de calidad del hospital de cruces al señor

los dos primeros desde luego cargos de confianza y amigos de los anteriores o entonces responsables del departamento de sanidad no pasan simplemente de facultativos señor erkoreka tenían una relación de amistad con los antiguos responsables del departamento de sanidad en su momento la fiscalía que ultima el recurso contra esta sentencia del caso margüello solicita penas de prisión entre seis y once años

y cifra el posible quebranto a las administraciones públicas en seis coma ocho millónes de euros se constata

adjudicaciones beneficiaron a unas empresas que pertenecen a amigos de los antiguos responsables del departamento de sanidad cuando estaba el señor inclán al frente del departamento y que estas actuaciones se dan continuamente en el tiempo pese a las continuas advertencias de legalidad el gobierno se persona como acusación particular pero hay que decir que cambia de criterio y renuncia a solicitar

por considerar que no existe un perjuicio económico lo que está claro probados de que un alto cargo del departamento de sanidad el señor elorriaga

a una empresa de su amigo carlos margüello facultativo de osakidetza jefe de calidad

cercanas en su momento tanto al viceconsejero como al señor consejero el señor inclán aprobamos la constitución de una comisión de investigación que tuve el honor de presidir que quiero decir que realicé un trabajo muy exhaustivo un trabajo muy duro un trabajo en el que

se probó y se aprobó lo que las conclusiones que hoy queremos que se ratifiquen señalaron en su momento las conclusiones de investigación

que fue rechazado el pnv no reconoce ninguno de los hechos analizados y negó en consecuencia las irregularidades existentes

en ese momento el consejero de salud el señor bengoa del partido socialista abre un expediente informativo que apuntaba a unas conclusiones que han sido

por numerosos informes de la comisión jurídica asesora del órgano de control económico del tribunal vasco de cuentas y por numerosos testimonios

en este parlamento queda probado

un conjunto de irregularidades reiteradas y continuadas en el tiempo que afectan a los procesos de contratación de diversos servicios sanitarios

que se producen incrementos de precios en los contratos que no se mantiene el periodo de vigencia de un año para que no se incrementen esos precios que se aplican subidas en las tarifas muy por encima de las subidas que se estaban produciendo en ese momento

que esas subidas de las tarifas se producen de forma absolutamente unilateral

contratación concertada en beneficio de unas empresas en las que participaba un grupo de personas

de la administración sanitaria de los responsables de la administración sanitaria en ese momento y lo más grave es que estas irregularidades

y fueron continuadas en el tiempo a pesar de las continuas advertencias de legalidad qué casualidad me he referido a las subidas de las tarifas

se señala que se ha reiterado que se utiliza de forma reiterada procedimientos que limitan la concurrencia y por lo tanto la competencia

vulnerándose la transparencia y desde luego con adjudicaciones por el procedimiento de emergencia sin la debida justificación

que a la vez realizaban actividades concretas no en un consultorio médico sino a través de empresas concretas y algunas creadas para gestionar las listas sanitarias que como dijo el señor azkuna y el difunto señor azkuna en esta comisión de investigación que algunos de los parlamentarios que hoy estamos aquí tuvimos

haber sacado la gestión de las listas de espera a una contratación externa la gestión de las listas de espera corresponde siempre a hacerla

contratos con empresas privadas pero la gestión de las listas de espera se gestiona desde la propia

coincidencia en las mismas personas en las actuaciones irregulares qué casualidad amigos

de los responsables en ese momento del departamento de sanidad bueno merece un capítulo aparte

que se benefició de la gestión de estas listas de espera que no se tenía que haber sacado nunca

prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido por eso en el dictamen de la cojua revisando de oficio esta resolución

nulo el procedimiento cuando se declara nulo un procedimiento administrativo es que está viciado de origen no es anulable es nulo

para dar dicha autorización a esta empresa como digo creada ad hoc

precisamente la gestión de las listas de espera

que se crea ad hoc para gestionar las listas de espera y ser beneficiosa de

contratos chocante también dicen las conclusiones que se derive a una empresa de reciente creación

la gestión de las listas de espera existe un perjuicio económico también señalaron las conclusiones a las arcas públicas pero que en ese momento no se podía cuantificar el perjuicio económico pero que la fiscalía ya cifró

millónes de euros también en las conclusiones se dice que resulta raro que las irregularidades constatadas se realizaran sin conocimiento

de los anteriores responsables de sanidad con el señor inclán a la cabeza no tengo por qué recordar aquí la foto en el parlamento vasco la carta firmada entonces por el señor inclán consejero de salud

hoy consejero de salud por la señora múgica que estaba entonces y que está ahora y que tiene también que responder a muchas cuestiones en relación a la gestión que está haciendo actualmente en relación a las ope de osakidetza porque este grupo quiere saber ya de una vez por todas

la lista de los exámenes al ivap para que haga los exámenes quién ha dado esa lista de expertos

en los indicios que se han constatado se ve claramente

están próximos a las personas que han hecho los exámenes y este grupo vuelve a preguntar hoy aquí quién ha proporcionado la lista de expertos en la ope de osakidetza al ivap para que haga los exámenes

esa foto en el parlamento vasco que se produce casualidad poco después

también otra trama de corrupción que está siendo enjuiciada en estos momentos con personas que tienen una vinculación y tenían una vinculación muy estrecha con el partido

vasco por lo tanto quedan probadas esas irregularidades en las conclusiones quedan probadas esas irregularidades continuas en el tiempo pese a las continuas advertencias de legalidad y nosotros sí que tengo que decir que este pronunciamiento no es nuevo y que en ese sentido la iniciativa no es

iniciativa que se aprobaba hoy se incluyera la ratificación de las conclusiones recogidas en el dictamen de la comisión de investigación y que se recogiera también una referencia

se recogían para que se pusieran en marcha por parte del departamento de salud ambas cuestiones han sido plasmadas en esta enmienda de transacción y por lo tanto

solo y que el partido nacionalista vasco que en su momento votó en contra de las conclusiones y las recomendaciones aprobadas por esta comisión de investigación no ha hecho ni un ápice ni un punto de reflexión y

bueno pues queda en evidencia

gracias presidenta y buenos días a todos voy a comenzar esta

respeto al caso margüello en la comisión de salud de hace año y medio los socialistas respaldamos en octubre del dos mil dieciocho lo que respaldábamos en febrero de dos mil diecisiete

porque lo que hoy volvemos a abordar fue trabajado con intensidad y rigor hace dos legislaturas lo fue con un amplísimo consenso y lo fue a impulso de quien tenía en ese momento la responsabilidad mayor para garantizar claridad y transparencia en las contrataciones públicas el gobierno que era un gobierno socialista

hizo lo que tenía que hacer con este y con otros asuntos que suscitaban cuando menos algunas dudas y esas dudas las pusimos en manos de quien debía la fiscalía

con un juicio y una sentencia que gustará más

pero que es como entendemos deben hacerse las cosas y de forma paralela a esta iniciativa desde lo parlamentario trabajábamos como decía en el estricto ámbito que nos compete

que estamos aquí hoy y participábamos en aquel acuerdo hayamos puesto el foco en ese punto porque somos conscientes

un esfuerzo que no puede ser despreciado sabiendo que llegábamos a donde podíamos llegar y donde entre otras cosas expresamente optamos por no fijar las responsabilidades que deben determinar los jueces y sí optamos por centrarnos en aquello que sí está en nuestra mano corregir las prácticas administrativas y en la administración pública así que primero una mirada en perspectiva y creemos que no debe ser despreciada como si nada se hubiera hecho ante la sospecha del mal uso del dinero público es importante la denuncia

no hemos estado con los brazos cruzados entendemos que los socialistas desde luego no y también es importante recordar que este parlamento y en lo referido al caso que hoy debatimos

y eficacia en el gasto público en las tres legislaturas en la que se denunció y trabajaron recomendaciones en la que se encauzó el procedimiento judicial y en el que se ha producido

que es en octubre del dieciocho por eso repito que quedan cosas por hacer pero es también verdad que en todo este tiempo se ha avanzado en algunas cosas para intentar

los hechos sobre los que trabajó la comisión de investigación y las conclusiones se produjeron antes de que desde el gobierno vasco se pusieran en marcha determinadas prácticas más exigentes para eliminar los espacios de sospecha en el uso del dinero de todos

porque no es malo recordar que aquellas iniciativas de mejora llevaron ya en dos mil doce a que euskadi obtuviera el máximo de puntuación en esta materia y que lo hiciera siguiendo los parámetros

como es transparencia internacional y que ahora en la valoración del dieciséis ha vuelto a tener ese reconocimiento

que también ha adquirido este mismo parlamento sobre el perfil del contratante y la publicitación de los procesos abiertos no dudamos que haya que hacer más desde luego seguramente hay que hacerlo pero existe también un compromiso por parte del actual gobierno y entendemos que hay que reconocerlo un acuerdo adoptado también por la actual cámara desde el primer pleno ordinario

profundizar en todos los mecanismos de control y de seguimiento del rastro de cada euro que los ciudadanos vascos dejan en manos de las instituciones y creemos que parte de las demandas de aquellas recomendaciones pueden verse satisfechas también

por tanto en lo que tiene que ver con esta iniciativa que nos plantea el señor uria y que hemos firmado cuatro grupos

era por todos conocida rechazo a cualquier forma de corrupción que implique un mal uso del poder público

ocultar o amparar dichos comportamientos cumplimiento de las recomendaciones planteadas por el dictamen de la comisión aprobadas el dieciséis de junio de dos mil once

atajar cualquier posible uso incorrecto de los recursos

por tanto como decía el señor uria seguramente los grupos parlamentarios firmantes de la enmienda transaccional hemos dejado todos pelos en la gatera pero los socialistas vascos entendemos que la enmienda transaccionada recoge la filosofía que todos planteábamos en nuestras enmiendas a la totalidad y por tanto el grupo socialista
se alegra del acuerdo alcanzado nada más muchas gracias eskerrik asko

en las adjudicaciones públicas que los acusados actuasen con el ánimo y el fin de beneficiar económicamente a las empresas de uno de ellos

eludiendo los principios de legalidad objetividad y publicidad que deben regir dichas adjudicaciones harrigarria da guretzat baina esan bezala sententzia onartzen

berresten ditugu sí nos reafirmamos en las recomendaciones de la comisión de investigación sobre el caso margüello y volvemos a insistir en el cumplimiento de las recomendaciones también aprobadas parece mentira que siete años después de la aprobación de esas recomendaciones tengamos que volver a ponerlo encima de la mesa por qué pues porque tenemos serias dudas de que todas

y hoy lo que toca es volver a recordar al gobierno que esta cámara considera necesario que se cumplan todas que se actualicen sí y que se cumplan todas

cuestiones como decíamos tanto el cumplimiento de las recomendaciones como la ratificación de esas conclusiones se recogen también en nuestra enmienda transaccional

de cuentas publicas y al gobierno vasco que es lo que hoy creo que toca beraz erantzukizun politikoa badago jaurlaritzaren aldetik zereginik badago

mamia azaldu dugula además de los puntos de la enmienda acordada por los cuatro grupos que acabo de explicar a los cuales también aprovecho

tres portavoces y adelanto que a nosotros sí nos gusta la enmienda otra cosa es que podría haber sido un poco más

firmado pues además de eso voy a mencionar otro punto el primero concretamente que no es más que una declaración de intenciones

una declaración de intenciones donde también denunciamos cualquier forma de clientelismo y corrupción que además siempre producen perjuicios en la sociedad a todos los niveles

es el punto cero de primero no de política de primero de cargo público es el punto cero de cualquier código

de venir adjunto a nuestra acta de parlamentario o parlamentaria y el cuarto punto donde se habla de la separación de poderes y el respeto a las sentencias que comentaba que incluía era en realidad la enmienda del grupo nacionalista de nuevo

en contra porque es de lógica por lo tanto sospechamos que los nacionalistas vascos que son los únicos que no han firmado esta enmienda donde realmente ponen objeciones

cuando hablamos de las conclusiones y de las recomendaciones de esa comisión de investigación baina

y así lo reflejan numerosos informes e índices que cuentan con indicadores objetivos que se encuentran muy lejos de lo que es la pugna política particular de este parlamento o la opinión política particular que tenga cada grupo de este parlamento uno de ellos

mencionado en otras ocasiones es el de la organización transparencia internacional en sus informes euskadi

y lo hace además con la máxima puntuación cien sobre cien pero no solo eso hace

hemos conocido también los resultados de índice europeo de calidad de gobierno que se conoce como

realizado por la universidad de gotemburgo por encargo de la comisión europea y en ese informe en ese estudio nos situamos prácticamente al mismo nivel que las diez primeras regiones de la unión europea y en primera posición como la comunidad autónoma con mayor calidad y menor

y en relación con el tema de la contratación sanitaria en relación con el tema del caso margüello respecto a los servicios sanitarios lo que

que se planteaba en la propuesta inicial no podemos olvidarnos del informe de la federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública

que también año tras año vuelve a constatar que euskadi dispone de los mejores servicios sanitarios obtiene los mejores resultados en salud

por lo tanto si hacemos un contraste aplicando indicadores objetivos

la realidad no coincide con lo que algunos partidos quieren transmitir a la sociedad edonola ere autokritika ere egiten dugu

tres personas han sido condenadas por el delito

por no seguir el procedimiento administrativo para la contratación de servicios que parece que a algunos se les olvida el único delito de los cuatro que se les imputaron

que es lo que usted ha afirmado del resto de los delitos

fraudes ilegales y negociaciones prohibidas a los funcionarios han sido todos absueltos

las decisiones judiciales como no puede ser de otro modo cuando nos gustan y cuando no nos gustan y además creo que es importante resaltar

señor cerdán ha sido absuelto de todos los delitos que se le imputaron inicialmente de todos los delitos que se le imputaron inicialmente por la fiscalía señora garrido de todos esan bezala gu ustelkeriaren

que no ocurrió que esos hechos no son ciertos y no ocurrieron beste aldetik eta baita ere

bakartxo tejeria andrea compañeros y compañeras yo agradezco al

al consejero jon darpón al lehendakari la mención reiterativa que

que fundé en euskadi que se llama osalde y que es la asociación del país vasco efectivamente

comparativamente ha quedado en el análisis que hemos hecho el mejor de los diecisiete servicios de salud del estado español y probablemente

no hay problema el problema es si algunas decisiones no solamente el problema lo confirmo

el problema es que partiendo de esta realidad por qué algunas cuestiones

o pueden desprestigiar al gobierno porque de lo que estamos hablando aquí el único que pierde

no se puede tapar la corrupción no se debe tapar el clientelismo en los temas de los jefes de servicios en los temas de margüello

no solamente la gente que trabaja en cruces que conocen perfectamente la trayectoria de juan carlos margüello

el ex consejero la gente se da cuenta de cómo está el percal

con argucias de abogados defensores o retirando las pruebas de la fiscalidad lo que es amiguismo clientelismo y corrupción

parlamentario orbegozo bajo el punto de vista técnico yo ahí no entro demasiado no soy jurista

éticamente se ha perdido una oportunidad de afianzar un buen servicio de salud de afianzar a sus dirigentes de contemplar de retirar cavernas antidemocráticas que existen en nuestra organización en osakidetza y en el departamento de salud hemos perdido una oportunidad pero

si a mí no me importa si yo soy una persona muy tranquila yo ya me fijo en la

de amplia tirada es que no se lo creen

los técnicos el departamento que han colaborado en este proceso de investigación pero esto qué es

entonces quién prestigia y quién no prestigia osakidetza el otro día estuve en una reunión de amigos

no os cargáis un poco el asunto de y yo les dije

siempre digo que defiendo el sistema público de salud que defiendo sus capacidades sus potencialidades y el trabajo de cada día de su gente de mis amigos y de mis amigas

pero defender osakidetza es democratizarlo es quitar a la gente que la destroza

y margüello perjudicaba el prestigio de osakidetza porque era un corrupto es así

y políticamente este gobierno ha perdido una oportunidad esa es la verdad

comparto algunas reflexiones que ha hecho el parlamentario orbegozo obviamente agradezco las reflexiones reiteradas y exhaustivas de la parlamentaria rojo de la compañera garrido

el nivel de unificación al que hemos llegado es inédito en este parlamento cuatro o cinco cosas claras el parlamento debe prestigiar sus propias decisiones y eso se llama omisión de investigación y dictamen de la comisión de investigación

lo que nosotros discutimos quién lo va a prestigiar quién juan luis ibarra quién nosotros y nosotras
nuestras decisiones y nuestros instrumentos democráticos de debate y este es el juego kerman no es otro eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

exigencia total claro que sí exigencia total pero cuando afecta al partido nacionalista vasco

hay que taparle pues mire es que hay casos de corrupción que afectan al partido nacionalista vasco y que el partido nacionalista vasco no puede dar la espalda a actuaciones que han sido irregulares como la que estamos hoy valorando y ratificándonos en unas conclusiones de investigación que fueron muy claras en donde se produjeron irregularidades claras en la contratación de diversos servicios sanitarios en osakidetza irregularidades de forma continuada en el tiempo

en el tiempo irregularidades que se produjeron pese a los continuos informes de legalidad

estamos hablando de informes que además luego corroboraron esas irregularidades estamos hablando de cómo se anula la autorización a una empresa creada ad hoc gestión de servicios sanitarios veintiuno para gestionar las listas de espera que vuelvo a reiterar

dijo que había sido una barbaridad que se diera a una empresa que pertenecía a una persona que era

se puede dar la concertación de determinados servicios sanitarios pero nunca la gestión de las listas de espera

de origen la autorización a esta empresa las conclusiones son muy claras son muy claras y el pnv hoy vuelve a dar la espalda a esas conclusiones como el pnv vuelve a dar la espalda también a otros casos de corrupción decir nada en relación por ejemplo al caso de miguel en donde afecta a personas vinculadas al partido nacionalista vasco donde estamos hablando de más de veinte delitos de veintiséis personas imputadas personas que han tenido altas responsabilidades en el partido nacionalista vasco ya vale

que el pnv no asuma ninguna responsabilidad en nada y que ante hechos que están constatados en los que se han producido irregularidades

la sentencia no es firme y usted sabe que no es firme

y qué delitos imputan a esas personas en las peticiones de la fiscalía y qué penas han solicitado

es firme y está pendiente de recurso y estas personas han sido condenadas por lo menos por prevaricación y estas personas eran amigas y tenían una relación personal con el señor inclán y estas personas no eran simples facultativos de

el otro día el señor erkoreka no uno era el jefe de calidad del

jefe de la sanidad territorial de bizkaia puestos que son de libre designación no me va a decir que no son puestos

decía el señor uria desprestigiar es que

y las posibles corrupciones y los casos de corrupción se desprestigian los sistemas

y vuelva a traer a colación el caso de la ope que viene a cuento

y no esclarecen actuaciones que tienen que ver con irregulares concretas

eso es lo que no quiere el partido popular y el partido popular lo que quiere es que se llegue al final y que cuando hay irregularidades que han sido constatadas y en este caso indicios de filtraciones en la ope de osakidetza

porque precisamente porque creemos en el sistema público de salud porque precisamente

mejor valorados porque precisamente es gracias

porque precisamente hay muchas cosas en juego y porque precisamente hay gente que se está jugando su futuro no puede quedar ninguna sombra de duda sobre el sistema

las responsabilidades de lo que está en juego desde luego si queremos que el sistema
sea un sistema de prestigio como está ahora siendo valorado por los ciudadanos eskerrik asko garrido

que en su intervención haya sido un poco más explícito que en su enmienda porque su enmienda era una declaración de intenciones es más una enmienda tipo que podría servir para el caso

las tarjetas black o para la gürtel era una declaración de intenciones sí que es cierto que usted ha sido más

yo por mi parte creo que no hay ninguna intención de unir a nadie con nada

que hay que aguantar su mochila y claro el señor erkoreka nos decía después del consejo de gobierno el día que salió la sentencia

no son altos cargos del gobierno pues no porque el ex viceconsejero no ha sido condenado pero bueno tenemos a josé carlos margüello ex jefe de calidad del hospital de cruces

fernández al menos creo si no estoy equivocada que una de estas personas es un cargo

verdad por lo tanto quién firma una persona el señor elorriaga quién firma el gobierno algún responsable del gobierno

supongo verdad bien entonces responsabilidad política la hubo

y no hacer así con la sentencia no respeto a la sentencia dicen

respeto a esas treinta y ocho reuniones y cincuenta y uno comparecencias que ha pasado el tiempo y que se han cumplido cosas lo tienen ustedes muy fácil cierren el capítulo vengan al parlamento

señores ha salido la sentencia del caso margüello esto se recomendaba

pero es que es que hay que llamarle al gobierno y cuando quiere el señor darpón nos tiene acostumbrados más o menos una vez cada dos meses a venir a explicarnos algo

a la comisión y cuéntenos qué ocurrió entonces cuéntenos qué es lo que van a hacer

ni con la famosa carta cada cual hace lo que considera y lo que quiere evidentemente y se puede entender que en algún momento pues

se posicione y luego sea de manera equivocada yo eso lo puedo entender pero dicen que rectificar es de sabios tampoco tengo que decirle lo que tienen que hacer pero bueno pues hay tres personas ahora mismo que están en el departamento

carta posicionándose a favor de algunos de los condenados por delitos de prevaricación que tampoco es cosa menor

por lo menos esta parlamentaria no admite la votación por puntos porque no es un impulso

bien esta negociación empieza el lunes

todos los portavoces incluidos usted también los cinco portavoces en un ejercicio creo

empezamos a negociar empezamos a hablar seis siete correos cruzados usted observador en destinatarios de observador

por lo menos no con este grupo me da la sensación de lo que ha hecho

a ver si podemos votar por puntos oiga las negociaciones creo que usted me conoce perfectamente no muerdo

creo que me conoce perfectamente y yo puedo entender que estemos negociando un punto y que en algún momento usted diga no me interesa continuar lo siento

pero no ha tenido ningún interés en negociar por lo menos con nosotras ni una llamada de teléfono ni una respuesta a los correos

ni una no ha querido negociar ahora me está pidiendo que votemos por puntos mire desde luego no me gusta jugar a ese juego y como a mí no me gusta jugar a ese juego porque realmente

así conmigo por lo tanto desde el convencimiento y con motivos

de que no hay que dejarle votar por puntos eskerrik asko eskerrik asko blanco anderea amaitzeko euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

hola estamos de acuerdo con la propuesta transaccional que nos pasaste el viernes sabes algo del resto de grupos

entonces esas razones para negarse a la votación por punto se la creerá usted desde luego nosotros no nos convencen ni mucho menos de todas formas se agradece que por lo menos haya respondido a la pregunta

no la aceptan en cualquier caso señor uria que ya ha habido juicio

tarde o sea dos semanas tarde cuatro semanas tarde varios años tarde no lo sabemos pero va usted tarde

los que conocen a margüello que uno es amigo del otro etcétera

repáseselos repásese las intervenciones modere un poco el lenguaje

una cosa es prestigiar y otra una cosa es prestigiar el trabajo de esta cámara y otra es hacer de aprendiz de brujo jugando a ser juez qué es lo que les molesta a ustedes que la sentencia le rebate todo el relato les rebate todos los argumentos

y de hecho han tenido la oportunidad para decirnos qué recomendaciones no se han cumplido por parte del gobierno nadie ha hecho ninguna referencia de las recomendaciones

qué no se ha cumplido nadie nadie ha venido aquí a aclarar nada porque les da igual

se quedan con las que les interesa y en cambio las importantes las de fondo la doce y la trece

la doce y la trece esas ni las menciona por qué porque una vez más les pone patas arriba el relato

la foto la famosa foto una vez más que no existe la foto es que no es verdad es que se basa en argumentos que no tienen ningún fundamento que no hay foto

de lo que ustedes dicen de lo que ustedes dicen precisamente lo contrario y además

señor uria es que me parece gravísimo lo que dice eso de convertirse en juez porque sí dónde están los derechos de las partes cincuenta comparecientes algunos vendrían a gusto otros en cambio vinieron porque tuvieron que venir qué sabemos de las filtraciones

dónde queda todo eso realmente se cree capaz usted de llevar a cabo un proceso judicial con todas las garantías en este parlamento que al final es un órgano político

gabe ese mensaje de excelencia en formación e investigación sin caer en el elitismo ese de una universidad para todas cómo

y ponía además como ejemplo en el artículo a una de las personas que creo que es más digna de admiración en nuestro país al catedrático de física y poseedor

pocas personas habrán alcanzado un mayor nivel de excelencia en su trabajo podemos recordar su trayectoria como consejero de educación y posteriormente su amplia trayectoria en el campo de la física

que la característica esencial de una universidad pública debe ser cuidar cuidar a los jóvenes y cuidar y formar a las personas y que ese cuidado es el símbolo de excelencia

excelencia en una sociedad sin elitismo eta ekimen honetan

la proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales que recoge

a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones

con su contribución de reforzar la identidad europea mediante la educación y la cultura

insta a los estados miembros al consejo y a la comisión a impulsar los trabajos relativos

y a estudiar posibles medidas dirigidas a abordar los retos que plantean las capacidades vinculadas con la digitalización

basado en el aprendizaje permanente hoy este parlamento debate e impulsa estos puntos

es necesario que el aprendizaje permanente se base en una estrecha colaboración y sinergias entre los contextos laborales y formativo en el segundo punto de esta iniciativa recogemos que hay que adaptarse

también el documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización también europeo reconoce la necesidad de nuevas formas de aprendizaje así como de una formación y de modelos educativos

pretende promover la creación de al menos veinte universidades europeas de aquí a dos mil veinticuatro y en esta fase inicial se propone poner en marcha proyectos piloto el documento

que colaboran más allá de las fronteras las nuevas universidades europeas compuestas por redes ascendentes de universidades deberían llevar la cooperación

desarrollen estrategias institucionales conjuntas a largo plazo en materia de educación

e innovación de la más alta calidad las universidades europeas deberían impulsar el desarrollo de programas de estudios abiertos y altamente integrados que combinen módulos

tiene un proyecto en marcha para que estudiantes puedan acceder a la formación y oposición requeridas en la enseñanza en los colegios públicos bilingües de francés euskera y francés occitano en estos momentos son doce los alumnos de la upv y la universidad de navarra que están en la universidad de burdeos estudiando en francés

con lo cual se capacitaran para presentarse al concurso de profesorado del estado francés para impartir docencia bilingüe asimismo también hay seis alumnos no euskaldunes de iparralde en zornotza aprendiendo euskera

del país vasco francés esta colaboración este proyecto piloto es una buena base para trabajar

vamos a ver estamos hoy con una moción que trae causa

de la contribución de la comisión europea al cito entre comillas refuerzo de la identidad europea a través de la educación y la cultura

el futuro de europa hacia un espacio europeo de educación en dos mil veinticinco

con este documento yo creo que todos estamos de acuerdo

habla del aprendizaje de idiomas

para fortalecer la identidad europea es más dice que establece el inglés como la primera y principal lengua extranjera a aprender que en algunos países

eso es lo que establece por qué de qué estamos hablando aquí estamos hablando de que los europeos podamos hablar entre nosotros podamos comprendernos podamos entendernos y en eso es en lo que hace énfasis

este documento es más dice que uno de cada dos europeos solo habla y entiende

y lo constata con mucha preocupación y solo uno de cada cuatro puede mantener una conversación en otras dos lenguas esto preocupa a la comisión europea y por eso nos habla de que

tenemos que tener una lingua franca es decir una lengua en la que podamos entendernos todos y ellos señalan el inglés

habla también del aprendizaje permanente como nos ha hablado la parlamentaria

pero también quiero decirles una cosa a veces hablamos de aprendizaje permanente y pensamos en las personas que se incorporan a la universidad en edad tardía etcétera etcétera no es en eso en lo que hace hincapié este documento el de gotemburgo también con preocupación

lo que constata es que el veinte por ciento de las personas en edad de trabajar en toda europa tienen bajos conocimientos de lectura escritura y cálculo estamos hablando del veinte por ciento de la

en edad de trabajar bajos niveles en lectura escritura y cálculo y el cuarenta y cuatro por ciento tiene poca o nula el diecinueve por ciento la quinta parte competencias digitales esto es lo que constata y de eso estamos aquí hablando

de formación continua y desde luego nosotros hemos sido firmes defensores y creo que lo hemos manifestado

como en las comisiones de educación de la enseñanza permanente de adultos y cualquiera que quiera hacer un esfuerzo en esa dirección desde luego contará con nuestro apoyo

la parlamentaria que me ha precedido habla de la movilidad delos jóvenes si queremos tener una identidad europea

y tienen que viajar y tienen que relacionarse

en estos momentos solo el tres coma siete por ciento de los estudiantes que podrían

y se pone como meta para el dos mil veinticinco el siete coma cinco por ciento de los estudiantes

y saben lo que facilitaría esto tremendamente saber inglés

y saber inglés lo facilitaría porque

seguirá o no seguirá en el marco de la unión europea pero irlanda sí

y lo mismo pasa en los países nórdicos que están dentro de la unión europea

también quieren uno coma cinco millónes de jóvenes en un cuerpo que se denomina

el cuerpo europeo de solidaridad en europa y fuera del continente es como una especie de

es una organización institucional

el inglés y fuera del continente el castellano porque hay muchos programas en sudamérica

seguimos dentro del erasmus está una parte muy importante que es

pues el etwinning que habla también de ello el documento es la mayor red del mundo de profesores desde infantil hasta secundaria es una red mundial

dentro de esta red y qué es lo que promueve promueve el aprendizaje inter pares el intercambio de proyectos hay más de sesenta mil proyectos en red y en el ámbito de la unión europea

permitiéndoles enseñar y aprender en otros países

el inglés en euskadi el cuarenta y dos coma ochenta y cinco por ciento de las ofertas exigen un idioma extranjero y de esas ofertas que exigen un idioma extranjero el noventa coma cuarenta y tres por ciento es el inglés

les doy en castilla la mancha extremadura galicia murcia navarra y la rioja el cien por ciento de los colegios

de los colegios en la red concertada enseñan ya inglés en el segundo ciclo de infantil y en euskadi bajamos al ochenta y seis coma ocho por ciento en los colegios concertados y al sesenta y siete por ciento

dejaré más datos para la siguiente intervención qué queremos decir con esto nosotros pues lo que queremos decir es que si apelamos para hacer una moción

debajo del paraguas de las recomendaciones europeas para conseguir una identidad europea a través de la educación y la cultura y para conseguir

europea para el año dos mil veinticinco vamos a necesitar el inglés y somos muy deficitarios en este aspecto y aprovechando que el pisuerga pasa por valladolid tenemos dos puntos

en esta moción que nada la moción habla del inglés que es el instrumento para poner en marcha las resoluciones y las recomendaciones publicadas en gotemburgo el año diecisiete pero es que en dos de ellas nos dice que el eje central en todos distintas propuestas tiene que ser el euskera

el euskera lo podemos fomentar lo podemos proteger lo podemos difundir pero no me lo metan en esta moción

nos está diciendo nos está hablando de la necesidad de tener lenguas francas que podamos entendernos entre todos y yo lo siento mucho hay un gran interés sobre el euskera en toda europa vamos lo hay en todos los sitios y por supuesto españa considera que el euskera también es una lengua española y por eso por ejemplo el setenta y cinco por ciento

lo cubre el ministerio de cultura entonces hay un gran interés y una gran protección pero lo siento en un ámbito

de entendernos entre europeos es que no es el ámbito para fomentar el euskera porque no responde a ese documento ese documento habla de las lenguas pero de las lenguas que sirven para entendernos entre europeos y no es descredito

que el euskera no sea una lengua para hacernos entender en el conjunto de europa no es descredito ni demerito

si estamos hablando del aprendizaje de las lenguas para poder crear esa identidad europea lo que no podemos pensar es que el euskera

en esta moción de esos aprendizajes de las lenguas comprendo que una ambición muy desatada y quizá

pero no veo muchas posibilidades de conseguir eso en fin en la siguiente intervención les daré más datos muchas gracias

batzuei buruz tengo que decirlo que al principio sí que nos había costado bastante leída la interpelación atinar

que se había hecho un poco al hilo del debate y de la negociación que hemos tenido para llegar a la transacción

el objetivo que desde euskal herria bildu se tenía en primer lugar aprovechar las recomendaciones que se realizaban por parte de la unión

estas recomendaciones que hay dos documentos que hablan sobre ese tema son recomendaciones

son útiles y creo que pueden ser utilizadas también para nuestro sistema universitario eso sí en las enmiendas que hacíamos alertábamos de un fenómeno que se está produciendo en europa y

nosotros y nosotras como grupo somos especialmente críticos y yo en primera persona porque participé en las movilizaciones que se realizaron en nuestro país en contra de la implantación

del plan bolonia reconociendo aspectos organizativos y pedagógicos novedosos que traía y reconociéndolos

pero siendo críticos con un modelo universitario que

como elkarrekin podemos pensamos que creo que es el momento más bien de

la universidad pública por eso nuestra enmienda hablaba exclusivamente en ese momento de la universidad pública del país vasco euskal herriko

con especial énfasis tal y como dice la enmienda dentro del sistema

la señora balluerka la rectora de nuestra universidad pública decía una universidad líder

en excelencia pero no en elitismo una universidad que tenía que ser de todas y por eso nuestra apuesta por la priorización de la

en materia por ejemplo de plurilingüismo la ehu tiene mucho que enseñar también a nivel europeo cumple con nota los estándares

y yo creo que el conjunto de la sociedad vasca la reconoce como liderazgo

ámbito tanto en investigación como avance científico y tecnológico y también

cabe decir y tiene mucho sentido en la moción que en ese espacio universitario de colaboración que se tiene con nuestros territorios comunes en cuanto al euskera creo que

para utilizar que son el castellano el inglés el euskera y el francés que creo que a nadie

lengua propia únicamente de estos territorios junto al resto pero es el origen y el uso del euskera se realiza aquí por tanto por eso

de valores decíamos introducíamos también en nuestra enmienda en cuanto a ese fortalecimiento de la upv incorporábamos y lo seguiremos haciendo en el plan universitario y en otras iniciativas como decía

ampliar esa oferta de asignaturas y titulaciones en otras lenguas y potenciar también esos trabajos también en euskera que también es una de las asignaturas pendientes recientemente con

esa asignatura pendiente que también es el desarrollo también de trabajos de fin de grado de trabajos de fin

en euskera también la promoción de dobles titulaciones y títulos conjuntos con otros socios estratégicos internacionales y tenemos una herramienta además que sin ir a otro tipo de debates tenemos una herramienta que la integración europea facilita que es la eurorregión

eurorregión que tenemos los territorios comunes del euskera incluso algunos más allá con ese nuevo departamento que se ha hecho en francia aprovechemos esas facilidades que nos da esa integración europea para

más cercana en nuestro propio territorio común del euskera y también

otras pues al final hemos firmado con

con nacionalistas vascos y socialistas vascos esta enmienda transaccional

universitario y ahí concretar también las propuestas que tenemos por parte de todos los grupos eskerrik asko eskerrik asko

otro tono que los puntos anteriores y

respecto a la educación superior y a nosotros nos parece muy importante esta nueva propuesta realizada por

de educación es verdad que esas recomendaciones no hablan solo de la educación universitaria y es verdad también que la intención de la proponente era poner el foco en la educación universitaria

sobre el sistema universitario vasco y más especialmente en la upv y a nosotros nos parece bien pero creo que es importante también resaltar cosas

que también destaca ese informe el informe destaca la importancia del conocimiento como recurso económico clave y se configura como fuente de bienestar para los ciudadanos la educación de calidad universal es un componente esencial del desarrollo personal cultural social y profesional en una sociedad

el derecho a la educación se concibe como no puede ser de otra manera como un derecho fundamental y la educación en todas sus formas y a todos los niveles debe presentar las siguientes características interrelacionadas y esenciales que son transversales a todas las etapas educativas disponibilidad accesibilidad y adaptabilidad

a una educación inclusiva de calidad es la clave para lograr una cohesión social continua mediante la lucha contra la pobreza la exclusión social de las personas con antecedentes

y los estereotipos de género por lo que sigue siendo la mayor ayuda a la movilidad social como se puede comprobar abarca aspectos muy amplios que incluso trascienden del mundo educativo el informe presenta recomendaciones clave

la modernización de la educación en el país vasco siendo estas recomendaciones extensibles a todos los territorios

que el espacio europeo de educación debe centrarse en la consecución de objetivos comunes incluyendo entre ellos la garantía de una educación de calidad para todos debemos entender y reconocer la educación como inversión en capital humano y que se lleven a cabo medidas para mejorar la calidad la inclusión y la equidad en la enseñanza y el aprendizaje

de los derechos sociales que ofrecen medios para reducir las desigualdades a través de la educación la formación

es esencial por tanto incluir en los programas educativos a todos los niveles por supuesto en el universitario también el aprendizaje basado en la investigación la actividad y la promoción de la cooperación debemos trabajar en el desarrollo del país

y su inclusión activa en el sistema educativo además de fomentar el desarrollo de sinergias y colaboraciones entre el departamento agentes sociales educación universitaria

que creo que es un aspecto que no aparece en la enmienda que hemos recogido pero que me parece un aspecto sumamente importante también siempre hemos defendido creo que todos el programa erasmus como el mayor éxito de integración europea y estamos a favor de fortalecerlo se necesitan más fondos para que más jóvenes puedan tener esta oportunidad

de los jóvenes que han participado en un intercambio erasmus afirman que se sienten más europeos desde esta experiencia es un programa que debe ser por tanto más accesible

a los más desfavorecidos y nos sentimos orgullosos de que nuestro grupo en el parlamento europeo haya defendido medidas como mantener la acción de los jóvenes restablecer la movilidad individual de los estudiantes de secundaria apoyar a la formación profesional y el aprendizaje

y el espíritu empresarial de los jóvenes tenemos que intensificar la cooperación entre la educación y la formación y centrarnos y reforzar las nuevas tecnologías

reducir los costes mejorar la transparencia y generar confianza hay que trabajar por tanto con el objetivo de desarrollar nuevas capacidades profesionales

entre otros en el quinto plan vasco de formación profesional también

en especial a los que plantea la cuarta revolución industrial

en propuestas concretas teniendo como horizonte el trabajo conjunto entre los centros y los agentes socioeconómicos hay que preparar a las personas para atender a la evolución

con todas las herramientas posibles para su desarrollo personal y laboral y es importante conectar el sistema universitario vasco por supuesto con la internacionalización

y la cantidad en la oferta educativa y sobre todo formativa yo estoy de acuerdo con la redacción se lo comentaba antes a la señora larrion

internacionalización y se habla de las terceras lenguas no hacer una referencia especial al inglés yo se que aquí nos vamos a mover básicamente en el inglés y en el francés por la ubicación geográfica que tenemos lógicamente pero creo que si alguna lengua en este momento se puede considerar lengua franca para todo el mundo es el inglés sé que usted comparte esa opinión pero quizás ha faltado una referencia específica en el texto a ese respecto no coincido sin embargo con lo que decía la señora bengoechea respecto

porque cuando uno hace la aproximación a la realidad europea la hace desde su situación personal desde su ubicación geográfica desde nuestra comunidad política y creo además que ayuda porque una comunidad como la nuestra

aprenden dos idiomas tienen mucha más facilidad no lo digo yo lo dicen los expertos para aprender una tercera o una cuarta creo que por lo tanto

las referencias que se hacen al euskera debemos fortalecer también por supuesto el cuarto plan vasco universitario para que dé respuestas y propuestas

sociales en la educación universitaria es verdad que la enmienda establece una referencia al sistema universitario vasco yo me alegro que se haya recogido también esencialmente a la upv

de la universidad pública vasca es decir de la universidad de todos de nuestra universidad más que ninguna otra no quiero que se ofenda las demás pero creo que es

como hemos visto recientemente como el tema de la educación

partiendo de dos elementos que me parecen básicos primero un diagnóstico compartido y segundo espíritu de consenso necesario para no convertir el campo de la educación en un pin pan pun de rifi rafes políticos

a la calidad del sistema educativo creo que este es el camino si lo que hacemos lo queremos hacer como predicamos por otra parte

satisfacción del grupo socialista por haber alcanzado este acuerdo que espero que sirva de ejemplo para que en todo el campo de la educación podamos ser capaces de hacer
acuerdos de esta misma manera eskerrik asko pastor jauna

herria garelako ere fue en noviembre de dos mil diecisiete cuando la comisión europea en pleno debate sobre el futuro de europa presentó su visión sobre cómo crear para dos mil veinticinco un espacio europeo de educación los líderes afirmaron entre otras que con un esfuerzo colectivo por parte

una agenda colectiva común y ambiciosa que tuviera a la

en el centro de la misma desde nuestro grupo consideramos fundamental aprovechar al máximo el potencial que tiene la educación para

con europa pasa esto por el fortalecimiento de la movilidad de estudiantes y de trabajadores también por

o de formación profesional así como también el reconocimiento y homologación de las diferentes titulaciones

algunos de los aspectos que se recogen entre las conclusiones de esta cumbre

que es el de inculcar a lo que es todo el ámbito educativo en su totalidad una clara visión europeísta y que creemos que además así lo consigue si bien es cierto que hoy nos estamos centrando en la educación superior

todos los ámbitos a fin de alinearnos con estas conclusiones creemos que es necesario hacer mención

en euskadi una de ellas es la ley del sistema universitario vasco una ley aprobada en dos mil cuatro y que ya entonces perseguía y está expresado además literalmente en su preámbulo insertar al sistema universitario vasco en el sistema europeo de la enseñanza superior como marco de referencia y también como espacio

de trabajadores y también de profesionales y es que en esta ley ya se recogían entonces en dos mil cuatro muchos de los aspectos que el año pasado la comisión europea extrajo entre sus conclusiones por ejemplo cuando hablamos de movilidad a través de lo que hoy en día es el programa

titulaciones que está recogida expresamente en el artículo cuarenta y seis de la ley

espacio universitario europeo que se recoge expresamente también en el artículo cincuenta y uno del texto azken finean lege honek oinarriak jartzen zituen euskal sistema unibertsitarioaren

y así se expresa en la propia ley de la administración pública de este país por llegar a un escenario acorde con el objetivo general del gobierno vasco de convergencia la unión europea y también con sus principios también en base a esa visión europeísta que comentaba al comienzo que tenemos desde nuestro grupo tampoco podemos olvidar decía que teníamos varias herramientas

que también creemos que en buena parte está alineado con estas recomendaciones realizadas hace un año por la comisión europea por ejemplo si hablamos de docencia e investigación cabe recordar que a lo largo de este dos mil dieciocho tanto el departamento de educación

un total de cuatrocientos doce millónes de euros a estas dos áreas lo cual entronca directamente con ese aspecto que se comentaba por parte de las conclusiones de esta cumbre de revisar la financiación de estos sistemas y que

supone un dos coma cinco por ciento más pero no solo eso no solo son ese tipo de datos sino que buena parte del plan recoge referencias expresas al ámbito europeo tanto es así que dedica un capítulo en completo el tercero capítulo titulado una estrategia alineada con

a todo este ámbito y se concluye además con una serie de retos que tiene que afrontar el sistema universitario vasco para responder

en concreto en europa tampoco podemos olvidar

que con una clara vocación europeísta que ya expresa que

con el ámbito educativo a nivel europeo por un lado está el desarrollo de una política de ciencia e innovación universitaria clara y que promueva el talento también continuar trabajando por un sistema universitario vasco con una gestión centrada en los resultados

apostar firmemente y aquí sí que directamente está entroncado con el tema de hoy por la internacionalización del sistema universitario vasco en su conjunto así como fortalecer el sistema de becas y finalmente impulsar los programas universidad empresa que cada vez están más en boga cuando hablamos de educación superior aún así

el objetivo principal era trasladar que en euskadi siempre hemos avanzado por una educación alineada con los principios planificaciones y normativas europeas porque así creemos que debe ser por una educación con un claro enfoque

debe ser también en el futuro porque al fin y al cabo en euskadi siempre hemos apostado por una europa que sea capaz de encontrarnos y no de enfrentarnos en euskadi siempre hemos creído que necesitamos una europa que sea capaz de formarnos y no de desinformarnos y en definitiva en euskadi siempre hemos estado del lado de la europa que avanza y no de la que retrocede amaitzeko

en primer lugar admitimos la importancia como parlamento vasco de la propuesta el futuro de europa hacia un espacio europeo de educación en dos mil veinticinco que es un poco

y para alcanzar los objetivos que se fijan y que salieron de esta cumbre creemos que debemos abordarlos desde una perspectiva de país y para ello que se involucren todos los departamentos agente sociales que tengan algo que decir

importante también con una clara vocación europeísta instamos a fortalecer los diferentes retos y propuestas en materia de cooperación en materia de digitalización en materia al fin y al cabo de los grandes retos a nivel europeo que están por delante y creemos que para ellos hay que utilizar una de las herramientas que tenemos que es el próximo

igualmente mostramos nuestro interés por el desarrollo de proyectos transfronterizos y en este sentido instamos al gobierno a que continúe desarrollando como viene haciendo hasta hora proyectos con la comunidad foral de navarra la mancomunidad de iparralde y que además como

creemos que debe ser y que es también parte de nuestra identidad y finalmente nos comprometemos como parlamento

como eje a apoyar el impulso de la internacionalización de la formación en el sistema universitario vasco en su conjunto y con especial énfasis en la universidad del país vasco

horregatik anbizioz nola ekitea etorkizunari señor pastor efectivamente de acuerdo con usted hemos querido centrar este debate en la universidad en cualquier caso la reflexión respecto

pero tampoco hay ningún problema en decir que de facto es nuestra tercera lengua

desde la unión europea ya hay que ir pensando en una cuarta con lo cual bueno pues tendremos que ir viendo pero en cualquier caso

y además evidentemente agradecer también al resto de grupos con los que hemos acordado toda la disposición

los que es la comunicación de la comisión al parlamento efectivamente hay un punto que hace referencia a cuáles son

pero es que hay un punto que hemos querido centrarnos más y ha sido lo que hemos traído aquí que son precisamente las peticiones del consejo europeo a la comisión europea que es esta hoja y es precisamente los puntos en los que hemos conseguido el acuerdo pero es que son los de mirar a futuro porque en lugar de volver a entrar en debates necesarios pero a veces también

también es necesario poner a futuro a dónde queremos llegar y el primero de esos puntos precisamente es que tiene que haber veinte universidades europeas de aquí a dos mil veinticuatro

la oportunidad de debatir eso de que por lo menos cuatro de los cinco grupos de la cámara lo veamos como importante y que tratemos también de que con el sistema universitario vasco consigamos tener una de esas veinte universidades sería dejar pasar un tren

que se haya dado importancia a esta iniciativa porque al final donde lo que estaba

bueno vamos a ver voy a contestar algunas de las cosas que se ha dicho aquí aquí nadie ha dicho que el euskera sea un oztopo un obstáculo porque lo no es

que es que sitúa al euskera como eje central en dos de los puntos y nos parece que cuando estamos hablando de un documento de la unión europea

de revertir la torre de babel todo lo que podamos poner el euskera como el eje central no favorece mucho la comunicación es esa palabra eje central porque nosotros sí somos una comunidad bilingüe y el castellano también es nuestra lengua propia

con muchos más millónes de personas que el euskera bueno vamos a ver al señor

que no nos hemos desviado del tema no hemos hablado del tema yo me imagino que usted conocerá bien el documento del que estamos hablando y ese documento no es genérico ese documento da puntos exactos no es obligatorio como

y luego hay otra cosa miren no podemos mentir a los ciudadanos yo no creo y a veces una se siente como que está pinchando globos de aire pero es que no podemos vivir del aire tendremos que vivir de realidades ustedes hablaban en su moción no la tengo aquí que una entidad que yo decía pero esta entidad cuál es hasta que me han dicho sí

ya lo sé y no es como ustedes le han puesto el título es la communauté dagglomération de pays basque es eso o sea

que se constituyó el uno de enero de dos mil diecisiete señores si la leen ustedes verán que su función si leen el documento de constitución es el trabajo intermunicipal entre los ciento cincuenta y siete municipios vascofranceses que la constituyen no tienen capacidad para otra cosa

de bayona buenos son los franceses nosotros tenemos mucha más capacidad en estos momentos tenemos tres instrumentos uno

porque de verdad aquitania tiene muy pocos muy pocas competencias luego tenemos

que está dando muy pocos resultados porque la parte francesa tienen muy pocas competencias

que es el que más ha adelantado en cosas como autobuses comunes deporte bastantes cosas pero es el que más ha adelantado entonces no digamos que vamos

gracias a ese método porque es que no es verdad

no es cierto esto es un órgano para que los municipios

se relacionen entre sí no mintamos yo siento pinchar esos globos

y vamos a ver y luego dicen sí porque el inglés como cosa natural lo damos por supuesto pues no lo den por supuesto porque solamente el catorce por ciento de profesores están acreditados para dar clase en inglés y eso

que si le pidiéramos el ce uno como en el resto de europa creo que bajaban al ocho por ciento entonces no lo demos por supuesto ni no sé qué

y en la ope del dos mil diecisiete para infantil y primaria de setecientos cuarenta plazas solo cincuenta y siete

con el requisito del inglés ya les digo hay veces que una se siente como la aguja que pincha el globo pero yo creo que no debemos vivir de aire debemos vivir de realidades y así conseguiremos avanzar mucho más conseguiremos avanzar

en la corrección del castellano y en la capacidad de expresarnos y relacionarnos con más de quinientos millónes de personas en la relación con europa

esas son realidades y lo siento mucho pero es que hay veces que oyendo estas cosas uno siente que hay muchos globos

pero en sede parlamentaria no se pueden dar por buenos hay que pincharlos gracias

legebiltzarkideok sailburuak egun on guztioi eta lo haré lo más rápido que pueda que ya

en su derecho al delirio que día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños
el mundo trata a los niños pobres como si fueran basura a los niños ricos como si fueran dinero isiltasuna mesedez y a los del medio

el mundo los tiene bien atados a la pata de un televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera

tienen los niños que consiguen ser niños y dicen las personas expertas en infancia

y eso es una tarea que nos toca abordar para que haya magia y suerte en la vida de todos los niños y de todas las niñas

un factor relevante para que el presente y el futuro sean una realidad que merezca la pena ser vivida y no una yincana de obstáculos en la que las mochilas de esas niñas y niños

de esas mochilas les impidan construir presente y futuro horrexegatik oraingo honetan elkarrekin podemos taldearen eskutik

todas estas actividades son el medio para cumplir con uno de sus principales cometidos que es la defensa de los derechos de las personas en relación con las actuaciones y políticas públicas

pero es suficiente teniendo en cuenta su cometido y sus funciones consideramos que siempre hay margen a mejorar y fortalecer el ejercicio de las mismas su línea de trabajo de evaluación de políticas públicas y su afección a la infancia así como los factores de vulnerabilidad

porque el ararteko cuenta con una oficina desde donde impulsa y organiza la actividad relacionada con la defensa y promoción de los derechos de niñas niños y adolescentes y por tanto existe ya experiencia acumulada ya de sobra en la temática pero es verdad que esta oficina

pero que lamentablemente no lo es esperamos que la enmienda transaccional que hoy logramos suponga de verdad poner en valor resulta realmente difícil

perdón intento continuar esperamos que la enmienda transaccional que logramos hoy suponga de verdad poner en valor la necesaria atención a todas las instituciones a la infancia y a la adolescencia a la institución del ararteko y al rol que pueda jugar este en la defensa y promoción de los derechos de niños niñas y adolescentes especialmente atendiendo a las recomendaciones que desde

por ejemplo sobre la situación de niñas y niños adolescentes extranjeros en la comunidad autónoma informes que se vienen emitiendo desde el año dos mil cinco

en un estado de derecho un agente clave para el ejercicio de la ciudadanía y por consiguiente

creo que hoy con este acuerdo damos un paso importante adelante ponemos en valor que lo que hacen no es solo importante sino preciso y es indispensable reforzar su trabajo pero no solo

es indispensable darle un impulso a este organismo porque es ley pero sobre todo porque lo reclaman los agentes que trabajan en infancia y es que lo he dicho

es indispensable que exista un entramado institucional fuerte y consolidado que se ocupe de sus derechos

instituciones que ejecuten políticas instituciones independientes también que supervisen y evalúen lo que se hace

que desde el parlamento continuemos poniendo en valor los mecanismos de evaluación y supervisión tanto internos como externos y especialmente ante los datos que tenemos de vulnerabilidad

la pobreza y la precariedad tienen en euskadi un impacto significativamente en las personas menores un diez coma cuatro por ciento de niños y niñas entre uno y quince años sufre problemas básicos de privación de los cuales un tres coma cinco

más severa los problemas básicos de privación se trasladan a que un cinco coma cinco de la población menor en euskadi no tiene acceso a ropa nueva

ocasiones especiales las carencias muy graves se traducen en que un dos coma tres por ciento de menores en ese intervalo de edad no tiene acceso a comida proteínica cada día y que alrededor de un uno coma cinco por ciento tiene carencia de acceso diario a frutas o no accede a un calzado adecuado hay otras carencias que si bien no afectan a las necesidades básicas son significativas porque tienen un impacto aún más destacado en el conjunto de la infancia en euskadi entre un ocho coma cuatro y un nueve coma cinco por ciento de los niños y niñas vascos

en actividades sociales externas que tengan un coste económico que son prácticamente todas pero la carencia más extendida es la imposibilidad de disfrutar de una semana de vacaciones fuera de un hogar

más del diecisiete por ciento de la población menor de euskadi en el año dos mil dieciséis a esta realidad

las llegadas de niñas y niños extranjeros que no están teniendo la adecuada acogida integral

las dificultades de acceso a la vivienda que tienen especialmente las familias con niñas y niños la segregación en las escuelas instituciones como la radio televisión pública vasca

ni siquiera la cara lanbide suspendiendo rgi a familias que no tienen más ingresos ni recursos pero sí niñas y niños que alimentar la inexistencia de informes de evaluación de impacto en leyes

todas las leyes que hacemos en esta cámara o un sistema de justicia por ejemplo que no tiene en cuenta a los niños y niñas debidamente ni en lo meramente físico como los espacios de atención

ámbitos seguro que si dedicamos un minuto a pensar a todas se nos ocurren muchas más circunstancias

precisa de ser atendida mejor y más adaptada a sus necesidades es por ello que para nosotras esto no es una iniciativa puntual en el día mundial de los niños

el nombre de un pacto preocupado por la natalidad más que por dar soluciones para nosotras la infancia tiene que ocupar un lugar central en la agenda es por eso

o el acuerdo que logramos para algo tan obvio pero tan ausente como

legal de incorporar el interés superior de la infancia en todas las políticas

acuerdo dicho sea de paso que parece que algunas y algunos se resisten a cumplir pero seamos positivas y pensemos que siempre hay tiempo para cambiar corregir revertir errores y seguir construyendo o eso esperamos adi egongo gara

que las vulneraciones de los derechos que afectan a la infancia tenían que tener un lugar central por ello y por primera vez a solicitud de nuestro grupo el ararteko tuvo ocasión de presentar su informe de manera específica y pudimos debatirlo tras esa comparecencia y después de ampliar y consolidar la información que ya manejábamos

en la necesidad de fortalecer su rol para la evaluación constante de la situación de la infancia y en concreto de las políticas públicas y de los factores de vulnerabilidad que les afectan

unánime que si bien no es lo que nos hubiera gustado desde luego es un compromiso político de todos los grupos de esta cámara que seguiremos de cerca cómo se implementa hemos alcanzado un acuerdo y aunque como decía es un buen acuerdo nosotras nos quedamos con algo en el tintero que es el compromiso para dotar

sea posible no hemos logrado en torno a ese punto nos deja preocupadas pero nos vamos a ocupar y desde luego en el tiempo presupuestario que se abre a partir de mañana estaremos pendientes de este tema entre los puntos acordados quiero destacar si bien no les voy a leer el conjunto de la incitativa

fundamentales ya que apuestan por fortalecer funciones que nosotras entendemos estratégicas el parlamento insta o solicita al ararteko más bien que fortalezca la evaluación de las políticas públicas y los factores de vulnerabilidad que afectan a la infancia y solicita también

para asegurar que la voz de las niñas y los niños está presente también en las actuaciones del ararteko cuestión que dio mucho de sí en la comparecencia que tuvimos hace dos semanas

de todos los grupos de esta cámara para aprobar esta proposición con un acuerdo unánime ha costado pero ha salido y es para estar satisfechas porque hoy de facto damos un paso adelante estaremos atentas para que no se quede en una simple declaraciones de intenciones besterik ez mila esker

recoge también que hay una creciente evidencia científica que sugiere que la mayor desigualdad de ingresos que se registra en la actualidad

juegue un papel importantísimo a la hora de determinar el nivel futuro eta horietaz gain eta guanche andreak ere azaldu ditu

de paradigma porque se comentó así cuando se presentó también el pacto por las familias y por la infancia iruditzen zaigu que desde esa perspectiva y desde esa perspectiva

como políticas transversales en esas líneas generales de las políticas públicas desde esa perspectiva de necesidad de evolucionar y de continua adaptación de las públicas a las necesidades y derechos de los niños niñas y adolescentes se hace necesario contar con instrumentos y cauces capaces de profundizar en el conocimiento de la realidad de la infancia y de la adolescencia de fomentar la investigación y el estudio

y sobre las demás entidades públicas y privadas que trabajan en el sector con el propósito de mejorar el diseño de las políticas en materia de infancia y adolescentes

y adolescentes no es la primera vez recientemente debatimos ya una iniciativa muy similar del mismo grupo parlamentario en concreto el diecisiete de mayo de este año difiere poco aquella iniciativa de la actual de hecho en la justificación

en ambas iniciativas se aprobó entonces una enmienda transaccional firmada por el grupo eh bildu elkarrekin podemos y el grupo popular el grupo nacionalista vasco y mi grupo el grupo socialista votamos a favor de los puntos uno y tres porque estábamos completamente de acuerdo y nos abstuvimos en el punto dos en aquella ocasión ya poníamos de manifiesto el interés

y a la necesidad de incorporar el principio del interés superior del menor en todas las políticas sociales y actuaciones de la administración pública

como no podía ser menos no estábamos de acuerdo con el punto segundo en aquel momento porque considerábamos que el estudio o el plan de incorporación dos mil dieciocho dos mil veinte que se pedía se pedía al departamento de gobernación y autogobierno y era el que nosotros no estábamos de acuerdo pero se aprobó aquel punto y en ese plan

con el ararteko pues bien a pesar de que también en aquel momento ya debatimos

en esta nueva iniciativa es crear un programa permanente para la evaluación de las políticas públicas y los factores vulnerables que afecten a la infancia y a la adolescencia

en el marco de la oficina de la infancia y la adolescencia dentro del ararteko y a continuación solicitaban recursos económicos para ello y nosotros

de acuerdo con esa necesidad de esa elaboración del informe permanente porque ya se realizan por parte del ararteko

anual y otro extraordinario a los seis meses ararteko recientemente en comisión ya señaló que consideraba suficiente también el seguimiento que en la actualidad se estaba realizando respecto de los menores y luego por otra parte

se ha avanzado porque se han ido acordando actuaciones como

se firmó el pacto vasco de apoyo a las familias y la infancia suscrito en enero de este año con eudel diputaciones forales gobierno vasco se

a esta materia y con posterioridad en junio de este año

interinstitucional de apoyo a las familias y a la infancia donde se incluyen también medidas concretas en esta materia y así se ha cumplido y lo recogido en el pacto de gobierno que se firmó al principio de

socialista además existe una obligación legal de llevarlo a cabo

del niño ratificada por españa en mil novecientos noventa y la resolución del parlamento europeo de ocho de julio de mil novecientos noventa y dos y se traspuso a nuestra normativa

y la ley tres barra dos mil cinco de dieciocho de febrero de atención y protección a las familias infancia y adolescencia en nuestra comunidad autónoma vasca creemos que hay herramientas suficientes para hacer efectivos estos principios y los derechos de niños niñas

dando pasos para mejorar en estas materias y es por ello por lo que hemos hecho un esfuerzo y realizado todos los grupos parlamentarios de esta cámara un esfuerzo para llegar a la enmienda transaccional que hoy hemos firmado y que se va a aprobar hoy

donde se solicita por parte del parlamento vasco al ararteko que se fortalezca la evaluación de las políticas públicas y los factores de vulnerabilidad que afectan a la infancia y adolescencia en el marco de la oficina

y a continuar impulsando estas acciones de orientación para una infancia saludable dirigida a los padres y madres y solicita

de la infancia y adolescencia que se han acordado y el parlamento por último insta al gobierno a que refuerce lo antes posible el observatorio de la infancia y adolescencia

nos parecía que podía ser importante yo creo que bueno con esta

pero lo que sí está claro desde luego es que único que hemos acordado durante toda esta legislatura en esta materia porque hemos debatido de una forma amplia sobre

etengabe estamos de acuerdo con seguir trabajando y destinando recursos materiales y personales para garantizar el bienestar de las niñas niños y adolescentes

y se trabaja en la búsqueda de una mejora continua es verdad que cada vez

y adecuadamente todo puede ser mejorado y con el acuerdo de hoy así

que todos nosotros y nosotras debemos garantizar y velar porque se cumplan y a veces uno de ellos se nos olvida que es el derecho que tienen a ser escuchados debemos escucharles comprenderles y tener en cuenta sus opiniones

muchas horas al día la conciliación es un reto y a pesar de lo que se ha avanzado todavía queda mucho por recorrer ante esto

a las familias para el cuidado y protección de hijas e hijos

para las ayudas en cinco coma cinco millónes de euros además este año las ayudas también estarán destinadas a los hijos e hijas entre dieciocho y veinticinco años que vivan y dependan económicamente de sus padres familia eta lan bizitza uztartzea sustatzeko laguntzak bi koma lau milioi eurora

bueno voy a dar una alegría a sus señorías y esta parlamentaria promete ser muy breve porque entre otras cosas

y sí que tengo que agradecer tanto al grupo proponente como a los grupos enmendantes la oportunidad que me han dado de participar en el acuerdo y tener en cuenta las aportaciones que desde este grupo que no habíamos presentado enmienda

nos pareció oportuna y tengo que decir además que recientemente también debatimos una iniciativa en relación

sociales y actuaciones de la administración pública yo creo que estamos ante una cuestión sensible

menores y los problemas que especialmente les afectan también aquí

lo datos que se recogen también en los in formes

de conocer y en relación también a la pobreza en el país vasco y cómo las situaciones de especial vulnerabilidad se dan además en las familias con niños el acuerdo adoptado hace hincapié en dos aspectos que nos parecen importantes fortalecer lo que tiene que ver con la oficina de la infancia y adolescencia del ararteko fortalecer su papel que yo también quiero aprovechar esta oportunidad

agradecer la labor que realiza el ararteko con sus informes e informes específicos sobre esta cuestión y por otra parte el acuerdo hace hincapié en el observatorio de la infancia y adolescencia

y creado especialmente en el decreto doscientos diecinueve

concretas y que es un instrumento claro para poder profundizar en la realidad de la infancia y adolescencia y en el impacto de las políticas que

de la ley señalada por lo tanto creo que la iniciativa oportuna el acuerdo también está muy bien y nada más y también pues como no hay mucho más que decir también me imagino que no habrá mucha réplica y que con esta intervención

réplica pero sí que considero que a pesar de que parezca que hay poco interés en esta cámara para hablar del tema hay algunas cosas que hay que aclarar y que hay que decir como decía

en lo divino no tenemos grandes desacuerdos en lo humano desde luego que sí que hay cosas que nos diferencian señora

lo de mayo y lo de ahora se parecen en que se habla de infancia digo lo que aprobamos en mayo y lo que estamos aprobando ahora

y externa del conjunto de las políticas públicas porque hay cosas

y le voy a poner un ejemplo muy concreto un ejemplo que además viene recogido en el artículo veintidós de la ley veintiséis barra dos mil quince de veintiocho de julio de modificación

las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos reglamentarios incluirán el impacto de la normativa en la infancia y la adolescencia

parlamento en ningún momento se ha dicho señora juez que no se hace nada

lo que sí se dice es que hay oportunidad posibilidad y sobre todo obligación de hacer más y de hacer mejor lo que pasa es que estamos siempre en que hay un problema muy grande y es que a este gobierno en general y a los grupos que los acompañan no les gusta que les digan que hay cosas que hay que mejorar

con las cosas en positivo me voy a quedar con que hoy llegamos a un acuerdo me voy a quedar con que tenemos oportunidad en el periodo presupuestario para trabajar y que estos acuerdos que llegamos en lo político tengan una traducción en medidas reales para mejorar la situación de la infancia en euskadi me voy a quedar con que los colectivos

entidades expertas en la infancia van a estar contentas con que haya una apuesta política entiendo

por mejorar los recursos y por mejorar las entidades que se encargan de observar que la ley se adecue y acompañe a una infancia más plena

porque a veces da la sensación de que no podemos traer iniciativas porque a algunas personas les molesta hablar de un tema que es tan amplio y extenso y del que le advierto seguiremos trayendo cosas besterik ez

hablábamos de los sistemas que están establecidos

que vive la infancia en euskadi y para la evaluación de las políticas públicas que se desarrollan en esa materia y yo en ese sentido lo único que espero lo único que espero es

nos decía la portavoz del pnv que se hacían cosas y que había que seguir haciendo efectivamente yo lo único que espero es que no se siga haciendo lo de siempre

euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza sí brevemente no pensaba intervenir pero

bueno lo voy a hacer muy brevemente señora guanche

el debatir sobre políticas de infancia y adolescencia y además he puesto de manifiesto la multitud de ocasiones que a lo largo de esta legislatura hemos debatido sobre el tema

a usted no le ha gustado que le diga que no estábamos de acuerdo con la elaboración o con la puesta en marcha de ese programa permanente por parte del ararteko

porque creemos que lo que se está haciendo ahora con los informes anuales y semestrales ya conllevan un trabajo continuado por parte del ararteko en esa materia pero sí estábamos de acuerdo en dar algún paso más por eso hemos hecho el esfuerzo

firmado hoy y lo que hay que poner en valor y lo hemos firmado porque le damos importancia a seguir dando pasos hacia adelante en estas

las actuaciones del observatorio de la infancia y la adolescencia yo creo que eso queda marcado en la enmienda transaccional

y eso es lo que hay que poner en valor lo demás pues bueno usted lo ha malinterpretado o no le ha sentado bien
es lo que es nada más y muchas gracias eskerrik asko